con hijos e hijas facilitar que padres y madres puedan dedicar todo el tiempo necesario

favorecer la emancipación juvenil y los proyectos de vida autónomos o en general mejorar la gobernanza de la política de familias e infancia en euskadi

plan berriaren helburua da hain zuzen politika positiboak handitzea eta zabaltzea la demografía y el apoyo a las familias es un reto de país es una prioridad para el gobierno y nuestro compromiso es incrementar los recursos en el nuevo plan de apoyo a las familias

ayudas al nacimiento y a la conciliación de la vida personal familiar y laboral políticas de parentalidad positiva mediación familiar servicio concilia

asesoría a empresas para introducir en sus estructuras medidas de conciliación y apoyo al consorcio haurreskolak euskadi es hoy con diferencia la comunidad que más ayudas destina a las familias también es cierto que las tasas de natalidad son muy bajas esto significa que debemos hacer más

extender y ampliar las políticas proactivas y positivas el pacto por las familias y la infancia cuenta con el respaldo unánime del consejo vasco de familia es un pacto de país y hemos firmado

donde las políticas familiares las políticas educativas y las políticas de igualdad de género se consideran clave para el desarrollo social y también económico estos compromisos nos van a permitir avanzar en la inversión en la infancia generar condiciones que favorecen la igualdad de oportunidades y de movilidad social

apoyar a las familias con hijas e hijos y facilitar el acceso de las mujeres al empleo remunerado y de calidad minorando la brecha salarial existente en la actualidad

mire conocemos los problemas señora kortajarena y les hacemos frente un dato

la renta de garantía de ingresos tiene menos perceptores pero mantenemos la inversión presupuestaria aun con menos perceptores mantenemos la inversión presupuestaria un ejemplo en euskadi doce mil personas reciben una ayuda pública para elevar sus salarios hasta la renta de garantía de ingresos

es responsabilidad de este gobierno no es un esfuerzo de este gobierno conocemos los problemas pero es innegable que euskadi ha recuperado el pulso invierte exporta crece

en media anual el más elevado en seis años y la industria ha sido

con un crecimiento del cuatro coma seis por ciento el mayor desde dos mil uno estamos mejor y queda mucho por hacer queda mucho por hacer

más y mejor empleo vamos a seguir trabajando para implicar a todos los agentes económicos

en este concepto de más empleo y de mayor calidad con el esfuerzo de todas y de todos tenemos clara la estrategia y el camino para responder a las necesidades presentes y futuras

egun on el pasado enero se abrió la fase oral del mayor caso de corrupción juzgado en euskadi el caso de miguel zoritxarrez

kasua gehienbat zeure alderdiarentzat la investigación de este complejo caso

que está siendo duramente cuestionada y está atacada

criticada por ello en otras ocasiones en las que nuestra policía ha sido atacada públicamente el gobierno vasco no ha dudado en salir en su defensa señor lehendakari

argitzeko y a partir de aquí señor martínez respeto al desarrollo del juicio y a las decisiones que adopte el tribunal respeto también a la presunción de inocencia de las personas juzgadas y desde luego respaldo absoluto

que ha contribuido en todo momento en todo aquello que le ha sido requerido el gobierno está personado en el juicio no nos corresponde valorar las palabras de las defensas ni los comentarios de la fiscalía no nos corresponde juzgar las estrategias judiciales de las partes nos corresponde defender el interés público y así lo vamos a hacer

la ciudadanía vasca se alegra de oírle decir que defiende el trabajo de la ertzaintza como policía judicial pero lo que realmente le gustaría a la ciudadanía vasca es creer

poder creer a su gobierno y poder creer a su partido el pnv y para eso necesita que las palabras y los actos digan lo mismo y no lo hacen porque

la defensa que hace su gobierno de estos presuntos corruptos de su partido

el manual de la corrupción que se basa en tres premisas primero que se niegue la importancia de los hechos que se diga que son casos aislados

en araba organizados en una trama y todos del mismo partido muy poco aislados el segundo paso es negar que el partido estuviera implicado decir que nadie

y diciendo que su actuación la del pnv ha sido ejemplar

del caso deslizar que no es un juicio justo deslizar

es excesiva callar cuando las defensas de estos imputados dicen que la ertzaintza no ha hecho bien su trabajo callar cuando dicen que no se ha custodiado correctamente las pruebas

o con las incautaciones de las pruebas y frente a estas graves acusaciones contra la ertzaintza

ha salido públicamente a defender el trabajo de los agentes del caso nadie de su gobierno ni usted

nada en defensa de estos agentes hasta ahora y lo peor es que tampoco

cuando esta misma semana ha defendido la inocencia de sus compañeros

su partido está tocado por un gravísimo caso de corrupción la ciudadanía vasca debe saber que hay veintiséis imputados casi todos altos cargos del pnv que es un caso con doce ramificaciones que van a comparecer más de ciento cincuenta personas veintiuno mil folios de sumario

señor urkullu usted no está siendo el lehendakari

esta siendo el lehendakari amigo de estos veintiséis imputados su gobierno está personado en la causa efectivamente como ha dicho pero mira hacia otro lado su papel no es relevante no está pidiendo penas contra los imputados está callado está

que su gobierno puede permanecer pasivo ante esta situación no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de un caso en que la impunidad en la que actuaban los miembros de su partido era total era grosera

contratos públicos cobraban facturas que han pagado todos los vascos y vascas por el trabajo que realizaron

la primera es que sus actitudes son reprobables ética y políticamente no cumplen con los mínimos que se nos exigen la segunda que nosotros sí
décimos alto y claro que el trabajo de la bukatu zaizu denbora bukatu zaizu denbora

andrea señor martínez le repito el gobierno está personado en el juicio no nos corresponde valorar las palabras de las defensas ni los comentarios de la fiscalía no nos corresponde juzgar las estrategias judiciales de las partes nos corresponde defender el interés público así lo vamos a hacer se lo he dicho en la primera intervención

eta erantzukizuna izango duzulakoan nago señor martínez como lehendakari como ex presidente del partido nacionalista vasco

en el ámbito institucional y político cabe recordar la rapidez

y el partido nacionalista vasco las personas ahora juzgadas cesaron en sus cargos en unas horas y cesaron también en su militancia ahora bien

y ahora estas decisiones han estado siempre acompañadas por el respeto al principio de presunción de inocencia y me va a permitir recordarle lo que hice lo que escribí lo que publiqué en dos mil diez el uno

días después de los hechos juzgados cuestión de principios esto es lo que publiqué

y se lo voy a decir las medidas impulsadas por los representantes de eaj pnv han sido inmediatas y severas

desconocemos el curso que vayan a seguir los acontecimientos deseamos que todo se aclare con la mayor rapidez y las adecuadas garantías para los

no nos corresponde juzgar la veracidad de las acusaciones sino adoptar unas medidas que salvaguarden

no ya solo el proyecto político del pnv sino la dignidad

hoy se está celebrando el juicio y el gobierno vasco va a hacer lo que tiene que hacer defender el interés económico público salvaguardar la presunción de inocencia de todas las personas respetar el trabajo y las decisiones judiciales y esperar

consejero el acceso a una vivienda digna es probablemente un problema fundamental para la ciudadanía en cuanto a la necesidad o al objeto de

en pareja el dos mil quince marca un hito histórico en la historia de este país con la aprobación por este mismo parlamento de la ley de vivienda una ley

respaldo por parte de esta cámara con el apoyo de grupos que hoy también están representados aquí una ley que consagra el derecho a disponer

y adecuada una ley que centra sus esfuerzos en la política de alquiler y en proteger a las personas más necesitadas a las personas que tienen

a esa vivienda me consta que el impulso en el desarrollo y aplicación de esa ley es uno de los principales objetivos de su departamento un objeto que compartimos un recorrido que no le voy a negar entendemos es tremendamente laborioso pero

con una amplia participación ciudadana de colectivos de movimientos de personas particulares un plan

en materia de vivienda y que también están trabajando en el decreto de reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda un hito uno de los pilares fundamentales que anteriormente le mencionaba como también están trabajando en la elaboración del decreto de acceso a la vivienda que establecerá los cupos para los jóvenes entre otros colectivos por tanto decretos de vital importancia para que esa ley tome cuerpo se impulse y verdaderamente

su compromiso con esta ley con su desarrollo no solo se traduce en esos decretos y en esos planes están ustedes trabajando en un claro impulso a las políticas de

de más de un cuatro por ciento en este dos mil siete con respecto al presupuesto del ejercicio anterior en el dos mil diecisiete nos consta que se ha producido un incremento de demandantes de vivienda en el registro

dos mil dieciséis y eso indudablemente tiene una implicación una clara implicación económica pero también tiene una clara implicación en todo lo referente a la planificación de su departamento por tanto a la vista de estos datos a la vista de este incremento del número de demandantes de vivienda en el registro de etxebide

cuáles son las causas de ese incremento de personas demandantes de vivienda en dicho registro eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta en efecto señor andueza durante el pasado año
se ha producido un importante incremento en el número de personas inscritas en el registro de etxebide como demandantes de vivienda concretamente en este ejercicio se contabilizaron un total de trece mil setenta y seis altas por lo que una vez corregidas las bajas

esta es la mayor subida en un solo ejercicio desde el año dos mil cinco al cierre de dos mil diecisiete el número de demandantes en etxebide pasó de los cincuenta y tres mil trescientos veintisiete

lo que supone una subida muy apreciable del catorce coma siete por ciento interanual

de los noventa y dos mil demandantes registrados en el año dos mil nueve de todos ellos optan por el alquiler cincuenta y uno mil ciento setenta y uno el ochenta y uno coma nueve por ciento y por la compra

esto es a la inversa de lo que ocurría anteriormente antes de la crisis en la que la opción mayoritaria era la compra

determinarlo con precisión lo más probable es que se deba a la confluencia de los movimientos producidos

acceder a una vivienda cuando antes no lo hacía y por otra personas que en los momentos más duros desistieron

y la apuesta asumida por mi departamento en favor del impulso a las políticas de vivienda en alquiler hay algunos detalles significativos

demanda por ejemplo el cuarenta y seis por ciento de las altas registradas el año pasado corresponden a menores de treinta y cinco años lo que nos indica dónde debemos concentrar una parte de los esfuerzos pero también es cierto que se ha elevado la edad media del total de demandantes que en un cuarenta y siete por ciento tiene entre treinta y cinco y cincuenta años

en cuanto a la tipología de los nuevos demandantes el sesenta y ocho coma seis por ciento de las altas del pasado ejercicio

que el porcentaje de divorciados y separados catorce coma tres por ciento se acerca ya al de los casados quince coma tres por ciento más allá de estos detalles hay una realidad que se impone cuarenta y seis mil setecientos sesenta y tres unidades convivenciales el setenta y cuatro coma ocho por ciento del total

detrás de estos datos hay personas y expectativas de vida y lo que nos demuestran estos datos es que existe en nuestro país mucha gente cuyas aspiraciones de vivienda no van a ser satisfechas por el mercado libre

cuya única opción de emancipación es una vivienda social en alquiler y esta situación puede ir a más porque con la irrupción de la crisis económica el nivel medio de los ingresos de las personas inscritas en etxebide se ha reducido

este incremento de la demanda nos indica también el importante esfuerzo que de forma mantenida tenemos que hacer desde las administraciones públicas para intentar dar respuesta a una demanda que está amparada por nuestra ley de vivienda

a todas las instituciones más trabajo más imaginación y sobre todo más recursos para atenderla de la forma más apropiada muchas gracias eskerrik asko

se imagina usted que en cualquier parlamento del mundo un gobierno remitiera un informe en el que se afirmara que la policía que depende de ese gobierno

que se practicaron de manera más allá de ser esporádica

usted qué cree que haría ese parlamento qué tendría que hacer entonces ese gobierno que afirma tal cosa no cree que entonces tendría que empezar a buscar responsabilidades eso es lo que han hecho ustedes y lo que han remitido a esta cámara y nos han traído un informe

se le ataca directamente en su honorabilidad en su derecho a que se presuma se suponga y se afirme que es una policía responsable que es una policía que lo que ha hecho a lo largo de toda su existencia es defender las libertades y los derechos

se imagina que además eso se pueda afirmar en un estado democrático de derecho donde hay un poder judicial independiente y un sistema de garantías donde no ha habido ni un solo caso de condena de un funcionario público de la ertzaintza por caso de malos tratos o de tortura yo

de que en sede parlamentaria defienda como creo que es su obligación su responsabilidad como lehendakari el honor

y que afirme que han sido perseguidos que han sido asesinados y que plantaron cara también a eta que es quien torturó que es quien extorsionó y quien mató en esta tierra pero ustedes remiten el informe porque están jugando a un juego de equidistancias

en el que hay una equidistancia entre violencias y en el que tienen que erigir víctimas de los dos lados y en el que quieren

fue un conflicto entre violencias distintas y ese juego tiene consecuencias y ese juego es negativo

y erosiona las instituciones democráticas que es lo que ocurre en este caso

que merece ser respetada y que merece ser defendida por usted y yo estoy seguro de que usted lo va a hacer pero entonces porque nos remite este informe al parlamento qué quiere que haga el parlamento con ese informe quiere que establezcamos como una verdad parlamentaria que efectivamente la ertzaintza torturaba cómo vamos a establecer eso ustedes tienen que retirar ese informe que se ha traído aquí y

y tiene que decir que eso no es verdad y yo le pido que lo haga como lehendakari porque me parece importante no solamente para usted para los que han estado sentados en ese escaño antes que usted para los que han tenido responsabilidades políticas en la dirección de la ertzaintza

y también para quienes hoy están vistiendo ese uniforme creo que es importante que lo diga pero para el conjunto de los vascos que tenemos derecho a pensar que nuestras instituciones han tenido siempre un comportamiento impecablemente democrático por tanto yo les pido

estoy seguro de que lo va a defender porque creo que no puede ser de otra manera y porque estando en el supuesto contrario cuál sería la consecuencia de todo eso por tanto le pido

esta mañana y que traslade un mensaje de apoyo de respaldo

comité contra la tortura de naciones unidas consejo de europa amnistía internacional

han expresado su preocupación ante los casos de tortura en españa

en ocho ocasiones al estado español por no investigar

en dos mil catorce realizamos el encargo al instituto vasco de criminología de la universidad pública vasca

presentado el informe considero necesario dejar constancia de tres realidades primera la investigación realizada

no ha recogido denuncias anónimas todas las denuncias tienen denunciante identificado y en muchas ocasiones han sido grabadas y

es que la policía vasca ha promovido estructuralmente un modelo preventivo positivamente valorado por las instituciones supervisoras y de derechos humanos el informe confirma la

la inexistencia de denuncia de tortura contra la ertzaintza por parte de instituciones internacionales inexistencia de condenas del tribunal constitucional o del tribunal europeo de derechos humanos por ausencia de investigación por ausencia de investigación tercera el informe no ofrece conclusiones caso a caso

y los malos tratos lo mismo ocurre con los informes encargados por el gobierno vasco sobre el impacto del acoso de eta

o el acoso a familias con el impuesto revolucionario informes encargados por el gobierno vasco

estas investigaciones han dado voz a las personas denunciantes y puesto el foco

partiendo de su testimonio se ha desarrollado una metodología rigurosa de contraste su resultado permite una reflexión crítica sobre vulneraciones de derechos humanos

el acoso a familia con el impuesto revolucionario la persecución a personas amenazadas

han existido y las victimas merecen que así sea reconocido

insisto este estudio permite comprobar que lo definitorio y lo estructural

por su modelo preventivo contrastado también por su disposición a colaborar con este estudio siempre con ese espíritu constructivo de asunción de responsabilidad mejora del servicio público y mayor garantía de derechos esta transparencia

es el mejor indicador objetivo del modelo de prevención que caracteriza a nuestra policía

lo que recomiendan las instituciones internacionales de derechos humanos eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna alonso jaunak ez du hitzik hartu behar

erabaki politikoak hartu behar dira tamainako erabaki politikoak una política una respuesta política mayúscula y no encogerse de hombros

y a lo que asistimos es a una ofensiva en toda regla por eso le voy a reiterar la pregunta de otra manera

si el estado español siempre se reserva la última palabra

no me mire a mí mire al resto de partidos asuma la responsabilidad señora iriarte

tiene con quién jugar tiene en el campo a los cuatro grupos parlamentarios que junto con ustedes tienen la oportunidad de alcanzar un acuerdo inténtelo usted también porque la responsabilidad es de este parlamento en su conjunto

se trata de buscar puntos de encuentro y poner el foco en lo que nos une el autogobierno es un bien común

respetar actualizar profundizar avanzar concertar eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

bueno visto el reparto de responsabilidades que acaba de hacer el señor urkullu no me queda otra que empezar saludando de una manera un poco

lehendakari imaginemos que una persona

presidente ordeak esaten zuena gobernuaren planen inguruan estamos dispuestos a invertir en país pero no vemos una estrategia clara

al mismo tiempo se habla de fondos de capital riesgo y cada uno de una manera diferente todo esto requiere de un debate y de una estrategia que diseñe las operaciones de las que se habla además

son supuestamente uno de esos supuestos socios a los que el gobierno

no se ha hablado previamente con las entidades financieras hay un batiburrillo de declaraciones pero no vemos estrategia plazos objetivos y quienes van a intervenir y cómo se van a conformar esto es demoledor porque ya digo no viene de un partido que tenga una posición supuestamente de exagerar o de subrayar los aspectos críticos y negativos sino de uno de los

a tomar parte de la política de inversiones industriales de este gobierno

en esta misma dirección y la última que tenemos todavía de este mes de enero después de la operación de capv es decir hace apenas quince días

estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta del gobierno vasco y a valorarla es decir estaban esperando a escuchar sus propuestas porque todavía al parecer no se habían dirigido a ellos a proponerles nada y claro es lógico que esté confusa la sociedad usted misma en la última comparecencia en esta cámara a la que se refirió al fondo de inversión que se quiere poner en marcha decía con los tiempos que estamos manejando a partir de primeros del año dos mil diecinueve

estaba dando en noviembre un plazo de dos mil diecinueve para la entrada en vigor de un fondo de un fondo que además no se iba a dirigir

aunque no se descartaba sino que se subrayaba que se dirigía a aquellas empresas de una cierta dimensión que requieren una ampliación de capital para poder ganar dimensión y para en un futuro incluso poder salir a bolsa no ya a esas empresas que estaban

usted misma en una entrevista ante las muchas de las que se ha referido

necesitamos un instrumento financiero al que no le vamos a poner nombre

mundu mailan dagoelako queriendo dejar claro que esa adquisición del uno coma veinticuatro por ciento

ni improvisada ni aislada se trata de una estrategia

que queda recogida en nuestro plan de gobierno y que responde a un análisis muy profundo de los instrumentos que tenemos en este momento y de los que nos quedan

se comentó tanto en el inicio de la legislatura cuando empezamos a analizar los objetivos del departamento como también en el análisis del plan de industrialización donde hablábamos precisamente y se lo voy a leer porque es un plan aprobado tal y como os comentaba ayer

impulsar un fondo de inversión público privado de doscientos cincuenta millónes para garantizar qué varias cosas por una parte el crecimiento

en todos los casos se den ambas circunstancias crecimiento y arraigo y en unas empresas muy concretas se dice con potencialidad tecnológica y presencia en mercados globales no me negará usted que precisamente la operación de caf se recoge

si algo caracteriza al gobierno en general y a este departamento en particular es que precisamente desarrollemos políticas públicas para conseguir que nuestra industria sea el objetivo principal de las mismas

en algunos ámbitos se califica como modélica y no lo digo yo se califica dentro de la comunidad europea y por organismos internacionales como la organización internacional del trabajo

vamos a decir ese mérito de haber hecho esto eso es mérito de muchos gobiernos que precedieron también a los nuestros y que hicieron una política industrial sostenida a lo largo del tiempo y el resultado es este una forma de hacer y una planificación que queda recogida tal y como le he dicho en el plan de industrialización pero también en el programa del gobierno y en el programa marco

por tanto trabajamos sobre una base de políticas públicas de larga trayectoria y adecuando los instrumentos a las necesidades puntuales de la empresa

que uno de los ámbitos desde la parte industrial se nos solicitaba una herramienta muy concreta

instrumentos financieros que permitieran un circulante para las empresas que se encontraban en crisis y qué hizo el gobierno poner a disposición esa herramienta hoy en día esa herramienta no es

no es estrictamente necesaria pero sí otro tipo de instrumento necesidades que son compartidas en muchos casos y que en otros necesitan también adaptarse a las

siempre en función de nuestros márgenes de maniobra evidentemente desde el punto de vista normativo por supuesto en función de disponibilidad financiera como no puede ser de otra manera y en función de posibles aplicaciones de articulaciones y no siempre es sencillo como usted bien sabe poder ser imaginativos y poner en marcha nuevos instrumentos que atiendan a diferentes necesidades la política de financiación empresarial en el gobierno vasco la llevamos de forma conjunta entre dos departamentos el que yo dirijo

hacienda que en este momento está desplegando también nuevos instrumentos de financiación que usted bien conoce también instrumentos que pueden ser de financiación de prestamos puros y duros de prestamos participativos tanto a través del como a través de eso que usted denominaba

es un instrumento financiero para atender a prestamos

que está más cercana a mercado y también para elementos de energías renovables de eficiencia energética pero también tenemos elementos que nos llevan a tomas de participación de capital en algunos casos tanto

como actuaciones de capital riesgo para crecimientos sean vía

tenemos dos fondos de actuación con la corporación mondragón que es una corporación diferente y que no puede

un amplio abanico de instrumentos que se ajusten a diferentes necesidades y en este momento estamos también de acuerdo a lo que se aprobó en el plan de industria haciendo una revisión en profundidad y una reordenación de los instrumentos que tenemos de los diferentes fondos para cubrir

y detectar aquellos en los que no estamos participando y es en este contexto donde se circunscribe precisamente ese fondo de actuación y donde teniendo la oportunidad de poder asumir ese uno coma veinticuatro por ciento

y donde tanto el consejero azpiazu como yo decíamos en cuatro meses estaremos en disposición de dar todos los detalles acerca de cómo será ese fondo y

desde luego que vamos a tener dos tipos de actuaciones eso se lo puedo adelantar

no con vocación de entrada y salida y recuperación de una cierta cantidad financiera sino con una vocación de permanencia dado el carácter estratégico de esas inversiones pero también esas otras actuaciones de entrada y salida porque pueden requerirse simplemente sustituir a un socio

necesita unos fondos y un socio diferente eso puede ser a través de este fondo que vamos a poner en funcionamiento o de adquisiciones o de crecimiento o de actuaciones internacionales y en esos casos sí será de entrada y salida

y será con carácter como lo son todos en el gobierno lo que se denomina un revolving

moción dependería del resultado de la interpelación de hoy de la respuesta a la interpelación de hoy y dije que salvo sorpresa que todavía no se ha producido

las cosas que yo le he pedido que me aclarase a través de esta interpelación y

es entonces cuando vendrá la moción pero no es una decisión predeterminada lo que pasa que muchos nos temíamos que efectivamente íbamos a salir de hoy

exactamente igual que como hemos entrado guk interpelazioan

que le daba igual el nombre del instrumento financiero yo le decía es que bueno el nombre es lo del menos lo importante es la entidad la esencia lo que queremos hacer porque un gato se puede llamar de una forma o se puede llamar de otra se puede llamar zuri o se puede llamar pepe pero es un gato y un gato es una cosa

pero la esencia de los dos es distinta no es lo mismo un fondo soberano que una ni que un fondo público privado y un fondo público privado ese capital privado puede tener una naturaleza u otra yo lo que quiero es que nos avance sobre qué ideas se está trabajando si es un

un objetivo institucional y no meramente de rentabilidad financiera por tanto se estará buscando y esperemos que así sea unos inversores que puedan corresponder y yo lo digo porque estamos preocupados porque como nos vamos enterando a través de filtraciones o de entrevistas o de apariciones en la prensa

pues cada vez de eso que podía haber sido un fondo soberano en un principio cada vez nos vamos alejando más y ahora ya el capital privado entra en un primer lugar en segundo lugar el capital privado entra y es mayoritario en tercer lugar se puede invertir también

y por tanto vamos asistiendo a una redefinición sobre la marcha

aquí el debate sobre cuál es el instrumento de inversión financiera que queremos tener porque antes reconocía que el gobierno tiene unas competencias y en el

esas competencias hay que respetarlas pero si en realidad no estamos haciendo un instrumento para un gobierno

sería importante que se buscará el acuerdo máximo acuerdo político social y evidentemente también con aquellos agentes interpelados a tomar parte en este fondo

nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno invierta a nosotros si algo nos parece criticable

es que nos parece que con esos doscientos cincuenta millónes no se cubre realmente el conjunto de las necesidades pero ciertamente es un paso

en términos generales no nos vamos a oponer estamos hablando de las formas y estamos hablando de luego la caracterización que luego se le va a dar y sobre eso si creemos que hay que ser trasparente y luego le hablamos

en el cual hay una pluralidad de fondos algunos de los cuales y usted me ha reconocido eso sí que se está evaluando algunos de los cuales tienen plazo de caducidad otros de los cuales son redundantes entre sí

a pesar de tener un buen objetivo y luego hay una serie de problemas estructurales por ejemplo a mi entender en los fondos de capital riesgo sobre la duración de las inversiones o sobre

ese capital desinvertido porque se han dado situaciones paradójicas como que nosotros hemos ayudado con dinero público a crear empresas los fondos de capital riesgo públicos salen

pero esas acciones se devuelven al mercado y efectivamente cuando se ha lanzado a una empresa

desaparece el riesgo y llega el beneficio lo público ha puesto el riesgo y lo beneficio

esos fondos de las empresas que se sacan adelante con capital riesgo público a otros fondos públicos con vocación más de permanencia por tanto uste dugu hemen badagoela eztabaida sakon bat

kapitala eta aipatzen zenuen gainera capital riesgo cuando existe el riesgo está el capital riesgo y cuando desaparece porque tiene y usted lo reconoce un tiempo

en cualquier caso sí quiero aclararle y empezando por el final que cuando se produce una desinversión en los fondos de capital riesgo que se gestionan desde la sociedad de gestión de capital riesgo precisamente si hay una característica es eso lo que le decía que son un fondo revolving es decir que yo puedo hoy invertir en una empresa a terminado el tiempo de inversión recupero ese dinero de acuerdo con las condiciones

y cuando se recupera ese dinero vuelve al mismo fondo si todavía tiene periodo de inversión y se continúa invirtiendo en el caso de que haya terminado el periodo de inversión

y que pueda continuar funcionando así ha sido cuando se ha constituido el fondo basque y cuando hemos tenido recursos además le hemos dotado de más recursos para que continúe funcionando

y donde las desinversiones que se hacen de acuerdo con las condiciones que se han puesto desde principio vuelven al fondo

de ese capital cuando hablábamos de la tipología de fondos me decía si es un fondo soberano me encantaría tener un fondo soberano y no parecerme al fondo catarí casi sino parecerme al fondo

es un fondo de un país al que nos gustaría parecernos en muchos casos y también en esto pero noruega tiene unos recursos naturales que por desgracia nosotros no tenemos o en algún caso parece que tenemos pero no sé si vamos a poder sacar en el futuro quizá los podamos sacar y podamos tener ese fondo soberano hoy

con los dineros públicos del nivel del fondo soberano noruego me temo que no vamos a poderlo tener por tanto vamos sí o sí a un fondo público privado que está además definido así en el plan de industrialización y está así en el plan de gobierno y le he dicho qué tipo de actuaciones va a llevar a cabo y creo que se lo he dicho claramente pero lo reitero dos tipos de acciones y eso es lo que va a definir el fondo unas actuaciones a largo plazo

lo importante no va a ser esa rentabilidad financiera sino la permanencia pero otras actuaciones con rentabilidad financiera porque tampoco me negará que si queremos atraer

donde los trabajadores tienen una parte hay que garantizarles una rentabilidad porque precisamente los trabajadores requieren de esa rentabilidad para que su epsv no pierda poder adquisitivo luego el fondo tiene que tener

esa doble característica sí o sí por las personas y por las actuaciones que se van a llevar a cabo de acuerdo con cada una de ellas se tomará en consideración si es una o es otra y no existe fondo en el mundo de característica privada

no haya que utilizar inversiones locales e inversiones internacionales con una mayoría local evidentemente pero no se puede prohibir porque la además así lo dice no se pueden prohibir inversiones internacionales porque garantizan esa rentabilidad

o cuando quiere participar en una inversión desde luego es imprescindible que tenga por tanto

son las que van a guiar el fondo y las que nos van a permitir definir quiénes son nuestros compañeros de viaje con los que se está hablando y de los que se está obteniendo algunas respuestas ya positivas pero desde luego a mí lo que no me suele gustar es vender nada de lo que todavía no tengo seguridad cuando tenga seguridad no tenga usted ninguna duda que tanto el señor azpiazu como yo lo contaremos en detalle eskerrik asko

han apoyado ustedes desde su departamento un proyecto interesante en vitoria gasteiz que es el bus eléctrico inteligente un proyecto innovador necesario para hacer frente al cambio climático para electrificar el transporte público en vitoria gasteiz un proyecto que nos permitiría desarrollar una tecnología propia y una infraestructura industrial asociada a eso y no tienen donde guardar los vehículos

incluir en el convenio que han suscrito las cocheras y esto sucede porque las prisas son malas consejeras querer hacer un proyecto para poder cortar la cinta en año electoral

hace que uno corra y se deje cosas atrás

conlleva eso un alcalde que es incapaz de cumplir sus compromisos y que además es especialista en estos temas de movilidad en enfangarse en cuestiones que deberían de ser de consenso y que sin embargo él las convierte en cuestiones de pelea electoral no hay más que ver

y ver cómo empieza este asunto a enfangarse también en la política municipal de vitoria gasteiz

hori bertan behera geratuko dela qué tenemos ahora cuál es la situación que tenemos tenemos un ayuntamiento el de vitoria gasteiz que tiene unas cocheras actuales que están obsoletas unas cocheras que generan quejas

por desorden por autobuses que ocupan las zonas de tránsitos de personas etcétera tuvisa que es la responsable de esas cocheras ahora mismo no puede afrontar

y esto nos trae a una cuestión que yo defendí en este parlamento hace unos meses que es la financiación del transporte público municipal

incidía en buscar herramientas para la financiación del transporte público municipal porque muchos ayuntamientos no tienen capacidad para financiar el déficit que todos los transportes públicos municipales tienen y vitoria gasteiz es uno de ellos

debido a las restricciones que nos marca europa o que nos marca el gobierno central no puede hacer inversiones más allá de lo que tiene permitido

sin embargo vitoria gasteiz sí tiene un proyecto de cochera municipal nueva un proyecto en los antiguos viveros municipales pero diez millónes de euros y no pueden endeudarse en diez millónes de euros porque el límite

del gobierno central es exactamente de diez millónes de euros por lo tanto esas cocheras municipales nuevas que necesita vitoria sí o sí no se van a poder construir sin apoyo externo y tenemos a la vez un proyecto que es el del bus eléctrico inteligente

cuya infraestructura y sus vehículos cuestan cuarenta y dos millónes de euros ustedes se han comprometido mayoritariamente a través de un convenio que nosotros nuestro grupo celebramos

foral de álava y ha incluido al ayuntamiento como socio minoritario este proyecto del bei

pero esos vehículos son trece unidades de entre doce y dieciocho metros de longitud que tienen que guardarse en algún sitio no se puede afrontar este proyecto a medias

hay que buscar un sitio no solamente donde guardar esos vehículos sino donde establecer la instalación de baterías que permitan recargar estos vehículos

que no incluye esas cocheras dónde van a guardar los vehículos

esa es la cuestión entonces tenemos por un lado a un ayuntamiento que necesita unas cocheras y no las puede pagar y tenemos por otro lado un proyecto conjunto interinstitucional que va a poner en marcha un autobús que no tiene cocheras donde guardarse es evidente

es necesario meter en ese convenio o establecer alguna vía para que los socios que van a desarrollar el bus

ayuden a costear esas cocheras porque de lo contrario tendremos un proyecto un buen proyecto que se queda a medias y tendremos una ciudad que necesita unas cocheras que no va a tener ese resultado por lo tanto el objeto de esta interpelación es saber qué van a hacer ustedes porque el convenio ahora mismo está en el parlamento nuestro grupo evidentemente

del contenido de ese convenio el plazo de alegaciones o de enmiendas termina o de oposición digamos termina el próximo día ocho

por su parte algún tipo de respuesta porque como socio mayoritario de este proyecto evidentemente tiene una responsabilidad que no es única que evidentemente a día de hoy les interpela directamente y es cómo vamos a hacer para que este proyecto como digo no se quede a medias y dé respuesta completa
al problema que ahora mismo de movilidad tiene vitoria gasteiz eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

en este parlamento el convenio que aprobó el consejo de gobierno el pasado diecinueve de diciembre lo aprobamos en colaboración con la diputación foral de y con el ayuntamiento de gasteiz ahora bien un acuerdo y un proyecto hecho con prisas

no no porque precisamente alguien podría acusarnos de lo contrario

estaba trabajando este proyecto luego llevamos más de dos años y medio trabajando intentando gestionar de la mejor manera posible la definición de lo que va a ser el bus eléctrico inteligente en gasteiz prisas ninguna

con mucho detalle y alguien insisto me podría acusar incluso de lo contrario el compromiso de todas las instituciones para con este proyecto después de haber hecho un análisis en profundidad del mismo asciende a cuarenta y dos millónes ochocientos cincuenta mil euros como usted bien sabe

con un compromiso financiero que empieza en dos mil diecisiete para el gobierno vasco

donde hacemos un reparto exactamente igual

en la gestión y la construcción del tranvía es decir un sesenta y cinco treinta y cinco sesenta y cinco por ciento el gobierno vasco además de que

preparación del proyecto hemos colaborado técnicamente en todo el proceso de licitación y vamos a continuar colaborando con el ayuntamiento en la ejecución del contrato de implantación con cargo a nuestros propios presupuestos de ahí que quizás usted vea unas partidas en ets puesto que

y el treinta y cinco por ciento restante lo financian entre la diputación foral de álava y el ayuntamiento de gasteiz a partes iguales además sí me gustaría señalar porque también ha habido algunas dudas de que el proyecto conlleva la implantación de autobuses cien por ciento eléctricos en ningún caso

cien por ciento eléctricos y el proyecto recoge y creo que

en diciembre creo recordar que era que este proyecto recoge obra civil recoge evidentemente vehículos

recoge automatización recoge un sistema de gestión inteligente y recoge un sistema de recarga un sistema de recarga que tiene una doble vertiente y también creo que lo conté en detalle una infraestructura de carga de oportunidad en dos paradas

del recorrido una recarga rápida con pantógrafo invertido con todos los recursos que no le voy a detallar en este momento que están perfectamente definidos ya y además un sistema de acometida eléctrica para hacer la recarga lenta en cocheras está perfectamente definido lo que va a necesitar cómo va a ser

cómo van a ser los conectores concretamente le digo cada uno de los conectores va a tener capacidad para cuatro vehículos ahora bien hay que señalar en este capítulo además que esas recargas tanto lentas como rápidas van a suponer una partida

va a recoger la extensión a las cocheras estén donde estén porque existen y usted lo reconoce de la necesaria acometida eléctrica y de toda la instalación luego no se nos han olvidado las cocheras puesto que las cocheras existen son propiedad de tuvisa y lo que vamos a hacer es introducir unos vehículos eléctricos

y el proyecto se va a encargar de tener esa gestión de esos vehículos eléctricos que es la novedad que se introduce además también estuvo

quién iba a encargarse de la gestión de esos autobuses eléctricos dado que si la puesta en marcha corría a cargo de un sistema o de una financiación a través de un convenio como lo era el tranvía quién iba gestionar eso si iba a ser tuvisa o iba a ser un sistema más

se acordó que puesto que era un autobús se encargará directamente tuvisa nosotros nos encargamos de ayudar de colaborar en la implantación pero una vez finalizado el proyecto

de tuvisa y los autobuses se encontrarán ubicados en las cocheras de tuvisa donde compartirán ubicación

o serán de gasoil según vaya decidiendo el ayuntamiento que quiere ir modificando esa flota de autobuses desde luego

en este momento consideramos que el transporte y en eso discrepo con lo que usted dice el transporte público municipal es precisamente municipal y por tanto tiene que ser cargo municipal que se encargue de poner en marcha el transporte que considere y de hacerse cargo del déficit

de encargarse de ese déficit que se produce porque si nos introdujéramos a poner en funcionamiento todo tipo de actuaciones en transporte municipal desde luego sería un no terminar porque como usted conoce tenemos muchísimos municipios

en los tres territorios históricos y en muchos de ellos existe un transporte público municipal por tanto yo creo que tenemos que hacer una reflexión de cómo gestionarlo en su conjunto y espero que además

pero no vamos a inmiscuirnos en otras competencias usted me dirá seguramente que el propio bus eléctrico inteligente no es competencia del gobierno vasco y es cierto

innovadora en la que introducimos electrificación en el transporte hemos considerado que podíamos

pero se trata desde luego por ser una actuación un tanto diferente y que puede ser no sustitutiva pero sí complementaria a un transporte como el del tranvía eskerrik asko

es lógico señora consejera que evidentemente ustedes no se vayan a meter en todos los asuntos del transporte

de ahí que nosotros hace varios meses propusiéramos atender a la financiación del transporte municipal precisamente para evitar que sea el gobierno quien tenga que ir pagar los fuegos de todos los municipios

porque es evidente que ustedes no pueden abordar todos los transportes y tienen unos transportes en los que son competentes y otros no y evidentemente en el bus eléctrico inteligente no son competentes ya lo sabe usted también es competencia del ayuntamiento pero volvemos a lo mismo el ayuntamiento no tiene dinero

presentó en comisión nuestro grupo apoyó públicamente y lo he vuelto a hacer hoy

como es en este caso háganlo bien no lo hagan a medias esa es la cuestión ustedes van a financiar el sesenta y cinco por ciento de este proyecto correcto la felicito a usted y al gobierno por dar ese paso pero háganlo completamente

porque entonces empezamos en la chapuza porque se rumorea se sospecha de que el señor urtaran está buscando por ahí un descampado para dejar los autobuses viejos de tuvisa que

trece unidades de dieciocho metros con sus correspondientes baterías

y ya hay un proyecto hay un proyecto de cocheras en los antiguos viveros municipales

y este proyecto existe lo que no tiene el ayuntamiento no es el proyecto lo que no tiene el ayuntamiento es el dinero y si no tiene el dinero lo que no podemos hacer es hacer un bus eléctrico inteligente para que los autobuses se queden en la calle

o se queden todo el resto de la flota de autobuses de vitoria

este es un problema que no es exclusivo del ayuntamiento precisamente porque ustedes han entrado a esta cuestión y lo único que les podemos pedir

es que hagan una buena gestión del dinero público porque

meten las baterías y la instalación de recarga en las cocheras antiguas más temprano que tarde cuando se construyan las nuevas cocheras vamos a tener que pagar

vamos a pagar dos veces la instalación de recarga de los vehículos y eso es una mala gestión del dinero público es una mala gestión del dinero público y es una mala idea lo que hay que hacer lo que entendemos en nuestro grupo que hay que hacer es

porque está justificado ir un poco más despacio para abordar conjuntamente todos los problemas y que si gastamos el dinero lo gastemos solo una vez y no dos veces

entiendo que no es una demanda exclusiva al gobierno vasco pero mi obligación es

de este proyecto y de este convenio que impulsan ustedes y lo que sí nos gustaría es tener una respuesta adecuada porque evidentemente no está en nuestro ánimo

dejar en evidencia que aquí existe un problema al que hay que dar una solución y entendemos que

no lo he hecho antes y sí le quiero agradecer a usted y a su grupo que efectivamente siempre han estado a favor de este proyecto

un elemento novedoso que nos puede dar además mucha experiencia para otras futuras actuaciones por tanto sí le agradezco el apoyo al proyecto

bien coordinado irnos hacia una parte más eléctrica menos contaminante y además analizar el tema de la financiación y cómo nos tenemos que unificar aparte de toda aparte de repartirnos las responsabilidades cómo tenemos que hacer que el ciudadano y ciudadana no sienta que está en un territorio o en otro sino que se encuentra dentro de la comunidad autónoma yo creo que tenemos grandes retos en esa ley y espero poderla trabajar en esta cámara

nosotros hemos acordado con el ayuntamiento con el municipio cada una de las partes de este proyecto que se ha ido trabajando en subproyectos tanto las obras que se van a hacer

el cómo implantar diversas actuaciones en ningún momento se ha planteado el tema de cocheras y yo espero que si esto resulta una dificultad tal como

se trabaje en primer lugar en el propio ayuntamiento y se haga un análisis de qué es lo que se quiere hacer

imponer sino todo lo contrario queremos trabajarlo de forma conjunta creo que así lo hemos hecho a lo largo de este tiempo de definición e insisto

el tema de las cocheras excepto que evidentemente había que introducir toda la electrificación toda la recarga

respuesta a las necesidades de estos vehículos eléctricos así como se ha definido cuántos vehículos de dieciocho metros cuántos de quince se van a definir en ningún caso se ha puesto encima de la mesa el problema de cocheras pero si existe entiendo que el ayuntamiento

el problema es que ese escenario o esos planteamientos son imaginarios están fuera de la realidad porque la realidad y los objetivos de la alta velocidad española no tienen

por eso mi pregunta hoy es cuáles son los verdaderos motivos para jalear animar acompañar promover estos proyectos que van en contra de las necesidades

alemania tiene dieciocho kilómetros de alta velocidad por habitante españa tiene setenta y nueve mayor del mundo en alemania

importancia primacía a las mercancías en españa a los viajeros

se ha hecho toda una nueva infraestructura de alta velocidad y en alemania se modernizaron las líneas que había en españa la línea es exclusiva para la alta velocidad

compartida con servicios convencionales de manera que hay un menor coste de las infraestructuras a cambio de costes de coordinación y en menos velocidad españa lo que ha hecho es

de ave y lo que ha hecho es destinar más del noventa por ciento del dinero en infraestructuras ferroviarias a la alta velocidad dejando desamparado el resto y la clave española de construcción es un coctel endiablado

y la tendencia a la financiación ilegal a través de las infraestructuras segundo punto ofrece

la clave y sí las mercancías hablemos de la velocidad no lo ofrece de hecho el gobierno de españa

una opción que era hacer hacer

entre iruña y gasteiz por donde ya existen las vías esta es la red que tenemos hoy esta es la red de ave que propone el gobierno de españa para euskal herria y esta es

si superponemos las dos entonces lo que vemos es que donde ya había una línea va ir una nueva plataforma eso es lo que vemos y la causa

no es que no pudieran ir las mercancías mejorando la vía que existe

y para el gobierno de españa era imprescindible que fueran a doscientos cincuenta kilómetros por hora que es para lo que se va construir

entre gasteiz iruña a ciento sesenta o doscientos cincuenta kilómetros hora es de ocho minutos es decir que para una diferencia de ocho minutos si finalmente

se van a gastar setecientos millónes de euros solamente haciendo la plataforma y ya nos vamos a los más de dos mil millónes de euros si al final se decide por la opción

entonces seguimos la red de alta velocidad española garantiza que haya un cambio de modalidad en el transporte de mercancías es decir ir sacándolas gradualmente a la carretera para meterlas en los trenes no

estamos de acuerdo y lo he dicho y todos los estudios de transición energética hablan hay un acuerdo generalizado hay que cambiar de modalidad sin embargo

y después de veinticinco años desde que se inauguró el primer tren de alta velocidad lo que ha habido es un diferencial negativo en españa

y ahora se transporta el cinco por ciento con lo cual la inversión en ave es directamente proporcional a la bajada de las mercancías por ferrocarril y aquí estamos en un dos por ciento todavía peor o sea que las mercancías en la red de alta velocidad española ni están

y usted no solo eso sino que nos habla de mercancías viajando llegando a madrid y viajando por toda la península en qué vías en qué vías

qué pasa que para que nosotros mandemos esas mercancías que tanto queremos mandar o que queremos recoger resulta que españa va a modificar ahora toda su infraestructura

eso es inviable es impensable y no está en la mesa de ninguno de los ministros de fomento ni va a estar entonces siendo eso así siendo eso así no conseguimos comprender cómo pueden dar por bueno el proyecto de burgos y gasteiz

y lo peor y lo peor de todo es que para justificar esto

es decir que treinta años después de que se diseñara todo el proyecto

nuestro cálculo para toda euskal herria está rondando ya no construir las plataformas sino poner todo en marcha está rodando entre quince mil y dieciocho mil millónes de euros usted me dirá si tienen otras cifras

bárbara no sabemos cuánto va a costar un billete por ejemplo

en talgo siete euros en ave veintidós euros a ver cómo va a competir eso

no sabemos cuándo se va a terminar no sabemos cuanto va a costar el mantenimiento no sabemos cuánto van a durar los trayectos porque ustedes en la página euskalit siguen diciendo que entre gasteiz y bilbo se va a tardar veintiocho minutos cuando el gobierno de españa lo que está diciendo es que va a durar cuarenta y tres minutos para cuarenta y cinco minutos que cuesta ir en coche menuda la ventaja y no sabemos

más allá del bocata de chorizo que lleve alguien porque mire usted los precios

entre cohesión territorial y la conexión entre capitales que son dos cosas muy diferentes

de varios ejes según madrid es el corredor

así lo explica el proyecto informativo según la red transeuropea es parte del eje madrid dax y si miramos los ejes prioritarios europeos es parte del eje lisboa

lisboa ya renunció a construir su tramo de tav y el comité de orientación de infraestructuras francés ayer mismo dijo que recomienda abandonar o posponer a un horizonte muy lejano

la nueva línea de alta velocidad burdeos dax es decir francia que tiene más de sesenta mil pasajeros por kilometro construido ha descartado todo esto

sí que hay porque está claro que el eje europeo no va a funcionar y la construcción nacional es esta la construcción nacional es esta lo dijo aznar muy claro hace ya bastante tiempo aspiramos a que a través del tren de alta velocidad todas las capitales españolas estén conectadas con madrid en menorsde cuatro horas por aquí si que puede ir algo de construcción nacional y ustedes

del ministerio de fomento en el dos mil doce recoge además precisamente esa alternativa que ha puesto en marcha o que ha puesto sobre la mesa el gobierno vasco

en el dos mil doce el plan del ministerio de fomento si nos referimos a la alta velocidad entre vitoria

realiza el ministerio sus primeros análisis en el dos mil dos hace el primer estudio informativo y lo aprueba en diciembre del dos mil trece ya es tiempo para

por tanto yo creo que como dice usted en su interpelación proiektu berri horiek hain berriak ez dirudite

asko esatea dela tanto el gobierno vasco como el ministerio de fomento por otra parte hemos acordado qué características va a tener

como usted bien sabe aunque diga que no es cierto la y vasca sí tiene esas características de tráfico mixto

y también lo tiene la conexión a iruña y hacia el mediterráneo porque sí se ha definido por ambos gobiernos por el gobierno vasco y por el gobierno de navarra así está recogido por tanto

hasta que ha llegado al tema del ancho diciendo que en alemania se mejoró la red existente claro porque ya estaban en ancho internacional claro como lo puede hacer francia por otra parte que ha renunciado a una nueva plataforma no así

de la que existe entre dax y hendaya léame todo lo que ha dicho ese informe léamelo completo no solamente una parte pero ellos lo pueden hacer porque tienen una red ya de ancho internacional en el estado español no existe y la única forma de hacer un ancho internacional es hacer una nueva plataforma que se puede hacer solo viajeros o viajeros y mercancías evidente toda la y vasca es viajeros y mercancías ancho mixto y así también es la conexión con navarra

qué ha ocurrido pues efectivamente que se va a desarrollar una nueva plataforma que solamente va a servir para viajeros y es ahí

no es suficiente para nosotros nosotros necesitamos que el ancho estándar continúe hacia el sur y ante la imposibilidad dado que el proyecto estaba adelantado de que en esa nueva plataforma se incluyeran las mercancías y usted estaba en la presentación y lo escuchó exactamente igual que yo

mercancías tal como había acordado con el gobierno vasco y con el gobierno de castilla león las mercancías irían por un tercer hilo en el ancho estándar que va a quedar liberado

por la red convencional introduciendo un tercer hilo para tener ancho estándar o ancho internacional y poder llevar las mercancías por allí estaba usted allí y lo escuchó exactamente igual que yo

pero sí por la introducción de ese tercer hilo

somos conscientes de ello pero para nosotros es prioritario que las mercancías no solamente conecten que vengan desde europa y vengan por cierto por esa autopista ferroviaria que se va poner en marcha entre gasteiz

y se pueda continuar hacía tanto el eje cantábrico como hacia lisboa hacia la meseta y hacia el corredor mediterráneo en estos momentos sabe usted que la conexión hacía iruña porque también lo comentó y estaba usted allí

con las dos alternativas previstas la de gasteiz y la de ezkio

porque hay que introducir un ancho diferente y una telecomunicación diferente y una automatización diferente y usted lo sabe también por tanto

completa modificación de esa vía y hay que introducir una vía nueva

las alternativas que existen en este momento son por gasteiz o por ezkio y cada una tiene sus dificultades cada una tiene sus dificultades en tiempo en funcionalidad en impacto ambiental

en este momento en estudio informativo y con todas las alegaciones estudio impacto ambiental y lo importante la conexión

de iruña hacía castejón y hacia el corredor mediterráneo que realmente ese mapa europeo que usted ha puesto sea una realidad a la mayor brevedad y que podamos llevar por ahí viajeros y mercancías las conexiones las consideramos desde luego para vertebrar territorio porque tenemos otro tipo

de que en estos momentos tenemos que trabajar en transporte y movilidad en capitales entre capitales

lo que se denominan regionales y de largo recorrido

tenemos diferentes modos de transporte no hay uno solo que responda no vamos en autobús a todas partes aunque podamos hacerlo no vamos en un tren de alta velocidad a todas partes aunque pudiéramos hacerlo y no vamos en un regional a todas partes aunque pudiéramos hacerlo para cada

tanto para viajeros como para mercancías y también

no me voy a escapar de otro ámbito muy concreto y me decía usted qué servicios a qué precio

y usted me ha hecho la referencia a un precio concreto mire madrid toledo porque también se puede hacer y también se puede utilizar y es bastante más barato y existen bonos y en este momento lo que se está trabajando con el ministerio y se está trabajando a nivel territorial es para que el propio euskotren pueda ser un operador que dé los servicios por ejemplo

aquí en la comunidad autónoma eso es posible sí si lo ponemos en unos precios y en unas formas de trabajar adecuadas sí y si usted mira el modelo alemán y deja de escuchar la del señor urruzuno que parece que salga usted y responda

alemania también está introduciendo alta velocidad para viajeros en exclusiva y si no mire usted la línea colonia que es bastante antigua eskerrik asko eskerrik asko tapia

hay es un debate largo y evidentemente el martes tenemos otro round

que dará muchas vueltas el asunto estábamos hablando de que a veces

se lo digo varias cosas uno la continuidad de las mercancías yo insisto y esto no me lo ha negado con lo cual entiendo que puede ser cierto

eso no está en ningún plan no está escrito ustedes ahora mismo de hecho incluso

lo que tienen es una nota de prensa básicamente que es lo que ha sacado el ministerio de fomento y unas bonitas palabras pero

lo que se está tramitando es decir la memoria informativa que está

dice varias cosas dice en la actualidad existe una línea férrea madrid hendaya que une las ciudades de burgos y vitoria y entre ambas ciudades se encuentra el nudo ferroviario de miranda esta línea actual se mantendrá en explotación como red convencional

tráfico de mercancías repito se mantendrá en explotación como red convencional en ancho ibérico para tráfico de mercancías y sigue hablando y dice

se contempla la creación del nuevo corredor de vía doble de ancho internacional indicado anteriormente para trafico exclusivo de viajeros

eso es lo que tenemos en realidad y usted ante esta realidad

y eso es como poco no decir la verdad yo diría algo más pero como poco es no decir la verdad eso es lo que tenemos

se estima importante la ejecución del proyecto necesario para así independizar de los tráficos de viajeros de largo recorrido con respecto de los tráficos de mercancías

aumentando la capacidad de la línea actual la capacidad de la línea actual que es en ancho ibérico y no en ancho internacional y usted decía que para hacer ancho internacional

cómo es que está dando por bueno esa promesa que no es otra cosa

actual existente yo creo que no yo creo que no cuadra por ninguna parte y por cierto ya que ha mencionado usted los ejes europeos

hay un eje que es el atlántico y otro eje que es el mediterráneo y la conexión

no es un objetivo prioritario europeo digo porque también es importante saberlo

es que yo creo que usted no ha puesto aquí ninguna razón que justifique que en lugar de hacer las nuevas plataformas de alta velocidad

no nos lleve a bogar por mejorar la red actual existente a hacerla también compatible con el ancho de vía europeo y sacrificar una parte de la velocidad que promete

una buena parte que no paga españa que no nos olvidemos que con eso también tendemos a hacer trampas que se pagan las infraestructuras vía cupo con lo cual lo pagamos entre todos si vamos

si vamos a gastarnos al final más de diez mil millónes de euros lo he dicho una y otra vez a nosotros el cálculo nos sale que por cada familia vasca

de inversión no que salgan directamente del bolsillo pero que la inversión por cada familia vasca es de quince mil euros y es así y se paga

y yo creo que aquí lo que está pasando es otra cosa que yo sí le creo a usted cuando usted me dice que

pero está pasando otra cosa y es que no existe el modelo alemán existe el modelo español pero hay una cosa que es peor que es al final

como no podemos reconocer que estamos en un lugar de subordinación y que es españa quien decide las infraestructuras y qué dinero nos va a poner en vez de unirnos para decir estas son las que queremos y estas son las que no queremos ustedes lo que dicen es ah no nosotros los conseguidores

de que se note y se evidencie que no estamos decidiendo porque yo sé que usted el proyecto que ha presentado el estado el ministerio de fomento no le hacía gracia y esa inocentada

en una aceptación lo que significa es precisamente ese tránsito en vez de aceptar que es una imposición

yo creo que ese es el motivo para estar aceptando este descalabro que tiene ya dimensiones bíblicas

sí es cierto que las redes de interés general los puertos de interés general los aeropuertos de interés general son competencia del estado evidente sin embargo

está el gobierno vasco quien estaba en el gobierno vasco en el año mil novecientos noventa y siete estaba definiendo cómo iba a ser la y vasca cómo iba a ser la conexión cómo iba a ser

los aspectos técnicos que hubo que pelearlos mucho con el ministerio de fomento eso sí se decidió aquí y eso no me lo puede usted negar el que exista una conexión con porque se le ha olvidado porque hay una conexión hacia navarra y mírelo usted en el mapa

la conexión de iruña con la y vasca está a través de ezkio le conmino a que lo mire porque está y eso lo define el gobierno vasco y lo acepta el estado

algo curioso quizá usted no lo sepa en este momento hasta burgos sí vamos a poder ir y luego entro en ese aspecto

porque madrid sevilla a pesar de que no se esté utilizando está preparado para ser tráfico mixto ya está preparado

no exista un operador de mercancías que tenga o que le interese utilizarlo pero preparado está luego

me hablaba usted de por qué aceptamos la solución burgos vitoria es verdad que a mí me gustaría muchísimo más

sin embargo el que se introduzca un tercer hilo es decir esa red convencional se va a poder utilizar en ancho convencional y en ancho internacional me parece una solución aceptable no es la ideal no pero es aceptable habremos llegado hasta burgos y nos quedará burgos madrid todavía porque una vez se lo he dicho desde el principio y hay que trabajar para que burgos madrid también se pueda llevar a cabo porque de madrid a sevilla ya es cierto lo que como gobierno nos interesa y creo que usted además comparte es que las mercancías se puedan llevar en ancho métrico y se lleven por euskotren por toda la cornisa cantábrica que se lleven en ancho ibérico porque no va a desaparecer de un día para otro y todavía las mercancías las vamos a tener que llevar algunas en ancho ibérico y también sea posible llevarlas en ancho internacional

para mercancías que nos interesa tener esa es la realidad que vamos a vivir durante muchos años no vamos a sustituir de un día para otro

pero vamos a dar los pasos para que sea posible y entretanto utilizar las infraestructuras que tenemos de la mejor manera posible para viajeros y para mercancías eskerrik asko

interpelación en relación a los recortes en las ayudas a las familias

a ver si era propósito del gobierno seguir con los recortes en las ayudas a las familias vascas teniendo en cuenta que el gobierno del señor urkullu el partido nacionalista vasco que criticó los recortes en las cuantías en las ayudas

por paliar o subsanar esos recortes y por lo tanto formulamos una interpelación en ese sentido como ustedes recordarán cuando empezamos la pasada legislatura no teníamos noticias del cuarto plan de familia el tercero plan de familia acabó su vigencia en el dos mil quince

no teníamos noticias de una estrategia para la infancia

además comprometida por el propio lehendakari en el pleno de política general del dos mil quince pleno horretan

ez genuen izan hau bi mila hamabostean izan zen tenemos que decir que a raíz de esta primera interpelación a la que hacía referencia sustanciada en febrero de dos mil diecisiete pusimos deberes al gobierno y llegó la evaluación del tercero plan

de los órganos institucionales

la estrategia de familia porque de la estrategia de familia emana

por lo tanto volvimos a presentar una interpelación también en relación

ocasión de debatir una moción en la que instamos al gobierno a remitir la estrategia a también elaborar el plan

las ayudas tengo que decir si es un compromiso del gobierno incrementar

de dos a tres años las ayudas por el segundo hijo pero sí tenemos que decir que este objetivo y este compromiso llega con muchísimo retraso porque era ya un compromiso y era un objetivo previsto para el dos mil catorce según

las bueno lo contemplado específicamente

este gobierno con más de dos años de retraso aprueba el pacto

suscrito entre el gobierno vasco diputaciones y eudel con retraso bi urte baino gehiago berandu etorri da kontuan izanik lehendakariak esan zuela

el lehendakari dijo en el pleno de política general que la estrategia de familia llegaría con brevedad en el pleno de política general del dos mil quince tenemos que decir que esa estrategia ha llegado con más de dos años de retraso pero esto sí tiene su importancia y esto

que no era desde luego el deseado porque por una parte

y por otra parte porque el consejero en plena precampaña electoral a propósito de un acto de parentalidad positiva

anunció y comprometió una inversión plurianual de doscientos millónes de euros a esta estrategia señora consejera no se le escapará

mientras no tengamos un plan donde se van a materializar esas medidas

pues no vamos a ver ese dinero y esa estrategia con ese compromiso fue anunciado por el lehendakari ya digo

electoral en el año dos mil dieciséis este plan interinstitucional

dos retos o dos problemas mejor dicho estructurales que este grupo lleva poniendo encima de la mesa no solo esta legislatura sino desde hace mucho tiempo y dos señales de alerta muy claras que tenemos

a la población en euskadi por una parte las bajas tasas de natalidad y los obstáculos que dificultan que nuestros jóvenes se emancipen y puedan iniciar un proyecto familiar y tener el número de hijos que desean y por otra parte hacer frente a la tasa de pobreza infantil

de las dificultades económicas que puedan tener las

otra vez poner de manifiesto desde el grupo popular la inacción de este gobierno la falta de ambición la falta de liderazgo la apatía en relación a las políticas

es señalado el retraso en la aprobación de los instrumentos necesarios para reforzar las políticas

desde que el lehendakari nos dijo en el dos mil quince que iba a llegar en brevedad retraso de la aprobación del cuarto plan de familia que acabó su vigencia en el dos mil quince

en relación a la atención infantil en relación a la educación por no decir el retraso en la aprobación del decreto que regula las ayudas por nacimiento y se pueda ampliar esa anualidad en las ayudas al segundo hijo

se materialice también y se pueda ejecutar el incremento presupuestario del partido popular que entre otras cosas era para este objetivo me imagino que también usted

sobre esto y espero que esté para aprobarse este decreto por no decir los incumplimientos en los objetivos del tercero plan de familia en los propios

fijados se hablaba que hasta los tres años se llegaría en el dos mil catorce no se ha llegado hasta los cuatro años en el dos mil quince y en los terceros hijos y

ninguno de estos objetivos ha sido cumplido por eso como decía queremos volver a señalar la falta de compromiso

el incumplimiento de los compromisos adquiridos y es evidente que vamos tarde que este gobierno va tarde tenemos que abordar sin demora todo lo que tiene que estar relacionado con la tasa de natalidad y el reto demográfico tenemos una de las tasas de natalidad más bajas

lejos de ese dos coma uno necesario para el reemplazo generacional lejos del dos coma setenta y cinco que teníamos de media en mil novecientos setenta y cinco

qué medidas se van a adoptar de forma efectiva y qué compromisos presupuestarios para impulsar las políticas de apoyo a las familias en euskadi eskerrik asko garrido

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi pues señora garrido para que no tengamos liderazgo a la hora de impulsar las políticas de familia y que hayamos sido capaces de que por unanimidad en el consejo vasco de familia

forales y eudel junto con el gobierno nos hayamos puesto de acuerdo todos junto con las asociaciones creo que

esto es una prioridad es una prioridad estratégica y vamos dando los pasos para que así se vayan

vayamos poniendo en marcha todas las iniciativas que tenemos que realizar para conseguir estos objetivos que yo se lo he comentado muchas veces señora garrido que tenemos que diseñarlos en el medio y largo plazo y que de la noche a la mañana no vamos a cambiar y que creo que euskadi y es justo reconocerlo

que más recursos que más ayudas y que más política

explicar en mi intervención en primer lugar y en relación al pacto de las familias suscrito el pasado dieciocho de enero

las tres diputaciones de eudel previamente aprobado en el consejo vasco de familia es un hecho que hay que ponerlo en valor y que constituye un hecho de especial trascendencia

y la infancia es la esencia que resume el documento de las bases de la estrategia vasca de inversión en las familias y en la infancia la aprobación del pacto por unanimidad en el consejo vasco de familia el pasado día veinte de enero no fue fruto de la casualidad

y conjunto entre los representantes de las distintas administraciones públicas y de las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de las familias

la enhorabuena por haber podido conseguir un pacto de estas características

que había sido demandado en numerosas ocasiones para cerrar ese pacto han sido necesarias múltiples reuniones que se inician el pasado mes de julio y que adquieren mayor intensidad a parte del mes de septiembre de este mismo año

que de una u otra forma están directamente alineados con nuestra estrategia de inversión en las familias y en la infancia

también se llevó el documento que sentaba las bases de la estrategia vasca de inversión

también hubo que trabajar este documento con distintos departamentos de otras instituciones como son las tres diputaciones forales y eudel y para ello también fueron necesarias muchas sesiones de trabajo

y de consenso la firma del pacto tras la elaboración de la estrategia de la inversión por la familia y la infancia que ha sido compartida con las administraciones y entidades del tercer sector

ha sido un segundo hito en todo este desarrollo este proceso culminará con la materialización del pacto y la estrategia

que tenemos previsto finalizar para la primavera del año dos mil dieciocho

y eso conlleva sin lugar a dudas un trabajo en equipo un trabajo conjunto un trabajo con consenso necesariamente buscado y no nos quedamos ahí porque es intención de este departamento que también los partidos políticos del arco parlamentario se sumen a este trabajo y participen de este proceso

en bilbao el próximo día nueve de febrero y el world café señalado para el día catorce de febrero en el palacio europa de vitoria gasteiz

analizar y priorizar las acciones que se incluirán en ese nuevo plan les invito a participar en ambos eventos para poder avanzar juntos señora garrido es

adoptar medidas efectivas y compromisos presupuestarios suficientes para impulsar las políticas de apoyo a las familias en euskadi evidente sino para qué vamos a trabajar tanto en ello no tenemos ninguna intención de perder el tiempo y que esto quede en papel mojado

ya el lehendakari anunció el pasado dieciocho de enero una primera medida que ya está en marcha y que la aplicaremos a lo largo de este mismo ejercicio consistirá como usted bien decía y sabía en ampliar de dos a tres anualidades las ayudas que por la segunda

actualmente las familias estas medidas supondrán un incremento adicional de cinco millónes de euros al año y un aumento del cincuenta por ciento de las ayudas que hoy reciben las familias

claro que tenemos un compromiso y lo demostramos pero este compromiso no es nuevo señora garrido ya trabajamos desde hace tiempo con la familia y con la infancia en euskadi se vienen desarrollando políticas de familia desde hace ya muchos años no en vano estamos realizando el cuarto plan de apoyo a las familias y repito que será publicó y que se verá

pero eso significa que ya hicimos anteriormente tres planes cuando desde el departamento de empleo y políticas sociales hemos asistido a la reunión inter autonómica convocada por la comisionada del gobierno del estado para el reto demográfico observamos que hay comunidades autónomas del estado que hablan con orgullo de su primer plan de familia ni siquiera lo tienen nosotros vamos por el cuarto con lo cual eso supone ya un camino avanzado y una positiva conciencia social

han venido asociadas a medidas concretas esas acciones hasta la fecha que hemos desarrollado en euskadi con diferencia nos ponen

se trata en el caso de las ayudas a las familias con hijos e hijas de las únicas ayudas de todo el estado que tienen carácter de derecho subjetivo

estas ayudas a las familias se han mantenido incluso en un contexto de grave crisis económica y sin embargo ya se lo he dicho alguna otra vez señora garrido nuestras tasas de natalidad son de las más bajas del estado lo que significa que una apuesta por las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas no es suficiente para que la ciudadanía vasca

hemos estado trabajando y apostando por políticas que trabajan la parentalidad positiva se ha impulsado la mediación familiar que ya en el año dos mil diecisiete tramitó un total

hemos promovido la conciliación responsable utilizando entre otras herramientas la página concilia plus

el año pasado recibió más de cuarenta y cuatro mil visitas además

hemos puesto una experiencia piloto que ha asesorado a tres empresas por territorio hasta lograr introducir en sus estructuras medidas de conciliación

y sus resultados son buenos también lo ha dicho el lehendakari en la pregunta que ha respondido tampoco podemos olvidar el gran trabajo y la gran labor desarrollada por el consorcio haurreskolak que depende del departamento de educación

e indispensable en aras de la ansiada y pretendida conciliación de la vida personal familiar y laboral el nuevo plan por las familias e infancia incidirá en fijar y establecer políticas positivas por la familia por la infancia

que ponga el acento en cuatro cuestiones en cinco cuestiones partiendo del respeto a la diversidad familiar garantizar unos recursos mínimos a todas las personas a todas las familias con hijos e hijas y prevenir la pobreza infantil para ello

desde las dos anualidades hasta las tres aumentando así el cincuenta por ciento

esté aprobado y que tenga carácter retroactivo a enero de dos mil dieciocho también hemos propuesto en la modificación de la renta de garantía de ingresos que busque dotar de mayores ayudas a las familias con hijos e hijas en segundo lugar en todas aquellas políticas que faciliten los procesos de emancipación y transición a la edad adulta de nuestra juventud también desarrollar políticas de parentalidad positiva

e implementar políticas de conciliación corresponsable que fomenten una organización del tiempo social más adecuada a las necesidades de la familias y que favorezcan la igualdad de oportunidades

y en este punto también estamos ampliando la experiencia piloto a treinta empresas diez por territorio y de distintos sectores de la actividad buscando implantar medidas de conciliación el nuevo cuarto plan señora garrido

de la primavera y contará con la colaboración y el apoyo de todas las asociaciones organizaciones empresariales sindicatos instituciones

no de esta parlamentaria sino de este grupo la tiene usted y además de una forma efectiva incrementando partidas concretas

en relación a las ayudas por nacimiento y asociadas a la conciliación lo que hace falta es que

luego ustedes agilicen todos los trámites necesarios

incrementos en las ayudas en este caso esa anualidad a los segundos hijos que como digo es algo

señora consejera permítame que le diga y que diga a este gobierno que los compromisos que adquiere el propio gobierno en sus propios planes o cuando nos dice el lehendakari que le va a llegar la estrategia en breve y estamos en el dos mil quince y llega en el dos mil dieciocho

dos mil dieciséis en plena campaña electoral que va a ver una inversión plurianual de doscientos millónes de euros vinculado a una estrategia que llega dos años

pues que todos esos compromisos de este gobierno los pongamos bastante en duda

ustedes los que tienen que hacer es abordar de una forma decidida

claras y con compromisos presupuestarios también en los presupuestos todas las medidas que son necesarias

el descenso va a ser de un veintidós por ciento recientemente hemos conocido ya algunos diagnósticos

de consultoras importantes de confebask nos hablan que tenemos un importante envejecimiento de la población la tasa de envejecimiento de la población dobla la tasa o el índice de juventud y que en los próximos diez años vamos a tener un déficit de cien mil trabajadores señora consejera estas no son cuestiones que se aborden de una forma lenta

pero ustedes tenían que haber ejercido ese liderazgo hace mucho tiempo ustedes saben porque

culminaba su vigencia en el dos mil quince la aprobación de la estrategia y ese pacto

esa foto el otro día entre todos los diputados y el lehendakari que vimos en los periódicos los tres diputados generales el lehendakari mucho antes teníamos que haber hecho esa foto y más cuando el plan

todavía no lo tenemos y deriva de esa estrategia usted me ha dicho aquí hoy el plan va a llegar

de buena fe y le voy a creer que va a llegar en la primavera

en el dos mil quince me reconocerá que llega muy tarde señora consejera

me reconocerá señora consejera que a día de hoy cuestiones concretas

de decretos o la modificación y aprobación de nuevos decretos están sin hacerse por la falta de diligencia de este gobierno por lo tanto señora consejera yo lo que le pido mayor liderazgo mayor ambición mayor diligencia más trabajo

que ya de una vez por todas ponga como prioridad absoluta políticas que son fundamentales

al reto de la baja natalidad que tenemos al reto que tenemos

al reto del envejecimiento de la población porque es que son problemas que está ahí no son problemas que vamos a tener

importante si no se toma medidas ya y vamos tarde señora consejera en relación

a través de numerosas iniciativas con propuestas concretas con incrementos presupuestarios de partidas importantes que hemos incrementado en dos años seis millónes y medio las ayudas por nacimiento que ya sabemos que no es lo único

el informe del ararteko del dos mil catorce también otras cuestiones pero esta sí que decía que era insuficiente por lo tanto

a veces cuando les oigo señores parlamentarios señora garrido parece que vivimos en un país que está en bancarrota que todo es

que da pena que casi es mejor marcharse de aquí y hombre sinceramente creo que no es verdad que no obedece a la verdad usted acaba de decirme catastrofismo que estamos en una situación

que euskadi va a desaparecer porque tenemos un problema de natalidad pues como el resto de los países desarrollados del mundo occidental y en eso estamos estamos trabajando

porque creo que hemos agilizado la tramitación de las ayudas hemos reforzado los recursos que tenemos para que las

y usted lo sabe hemos estado trabajando en el nuevo decreto y sabe cuánto tardan aquí en esta casa el tramitarse un nuevo decreto la siguiente es una pregunta en relación a por qué hemos tardado a la hora de tramitar una ley de juventud

la seguridad jurídica que nos obligamos para que

y creo que en breves fechas tendremos este decreto que va facilitar que las personas puedan tener ese incremento de las ayudas del cincuenta por ciento así que señora garrido acúseme de otras cosas pero no de falta de diligencia

este plan va a intentar romper con la transmisión intergeneracional de las desigualdades consagrando el principio de igualdad de oportunidades y de movilidad social

no solamente hay que hacer políticas de natalidad hay que hacer otra serie de cuestiones una de ellas será la natalidad pero hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con la juventud con el empleo con la vivienda

lo veíamos hace unos días en el diálogo ciudadano que compartíamos la comisión europea y el gobierno vasco en bilbao europa no solo es una unidad económica o de mercados europa se perfila como una unión de estados y países en la que la persona la justicia social

la sostenibilidad y el respeto sean los principales valores sociales y de ahí que la familia y la infancia junto a nuestra juventud juegan un papel fundamental

todo ello sobre la base de reconocer la importancia de las familias como núcleo básico de la sociedad como núcleo de la relación humana educación social afectiva y comunitaria

tal y como nos lo reconocen fuera lo importante

ahora se trata de adoptar las medidas efectivas y los compromisos presupuestarios suficientes para impulsar las políticas de apoyo a las familias el apoyo a la familia e infancia constituye una prioridad para el país

así lo recomienda el señor macarrón no sé si usted lo conoce director general de la fundación de renacimiento demográfico que participó

en el senado y quien dijo que este asunto en particular o se deja fuera de la política de partido o no se resolverá y yo estoy de acuerdo con esta afirmación

para que se produzca un incremento en la natalidad para el futuro del país entre todos hemos realizado un diagnóstico compartido

tenemos claro los objetivos que queremos alcanzar definidos en el pacto

al margen de situaciones coyunturales tanto políticas como económicas nos enfrentamos a un reto demográfico prioritario para este gobierno

por la parte de la política sino que debe abordarse también por la sociedad civil y en segundo lugar creo que debemos con rigor sin partidismos porque si no así corremos el riesgo de dar soluciones fáciles pero no eficaces señora garrido evidentemente
es propósito de este gobierno adoptar medidas efectivas y compromisos presupuestarios suficientes para impulsar las políticas de apoyo a las familias en euskadi eskerrik asko

decía usted que la pregunta era por qué han tardado tanto

de marzo del dos mil diecisiete begira bi mila hamairuko azaroak hamairuan

y exactamente decía se insta al gobierno vasco a elaborar la ley vasca de juventud de forma conjunta entre los diferentes departamentos del gobierno que desarrollan o deben desarrollar políticas que afecten a este colectivo la elaboración de esta ley deberá estar supeditada a un proceso de participación en el que podrán colaborar ciudadanas y ciudadanos a título personal y colectivos asociados a través del consejo

de euskadi y por supuesto en colaboración con las diferentes administraciones pero ya en dos mil dieciséis en contra de toda lógica el gobierno vasco pasó palabra ni caso a la primera y más importante recomendación de la ponencia

se aprobó en este parlamento una enmienda transaccional a iniciativa de elkarrekin podemos

antes de que acabase el año dos mil diecisiete febrero de dos mil dieciocho

y hace caso omiso al mandato del parlamento vasco entonces la pregunta señora artolazabal es porqué no ha cumplido el gobierno vasco con el mandato del parlamento
en lo que se refiere a elaborar la ley vasca de juventud antes de que finalizara el año dos mil diecisiete eskerrik asko eskerrik asko

a que elaborásemos una ley vasca de juventud antes de que finalizara el año dos mil diecisiete ya en aquel debate los grupos que sustentan al gobierno vasco

y como usted ya sabe en el programa legislativo de la actual legislatura no aparecía la redacción y tramitación de esta ley

imposible el cumplimiento del plazo de aquella proposición no de ley ya que la tramitación interna y los informes que se deben solicitar para elaborar un proyecto de ley se dilatan en un periodo

además en la comparecencia que yo personalmente realice en comisión parlamentaria el veintidós de mayo expuse como sí estábamos trabajando en el borrador de ley y reitere que no era factible cumplir con ese plazo solicitado por la iniciativa

una fase previa en la cual es necesario realizar un borrador y tramitar una consulta pública en segundo lugar hay que iniciar un proceso y esta fase consiste en la firma de la orden por parte de procedimiento por parte de la consejera o consejero la orden de aprobación previa

en la fase de instrucción se requiere de otro trámite de audiencia e información pública la solicitud de los siguientes informes preceptivos

de la comisión de gobiernos locales del consejo económico y social del informe de control económico normativo

es necesario aprobar una memoria suscita del procedimiento seguido y la aprobación del proyecto por el consejo de gobierno

como mínimo como mínimo son necesarios diez meses desde que se dispone de un borrador de la ley estamos trabajando en ese borrador de la ley y esta es la razón por la cual nos resultaba imposible cumplir la proposición no de ley que ustedes presentaron y ya lo advertimos ya les dije que era

exigiendo a pesar de que no se encontraba en nuestro calendario sí que nuestra juventud constituye una prioridad y en este primer año de gobierno hemos impulsado diferentes medidas

ya lo conocemos pero muchas gracias de todos modos no es excusa ya que esto como le decía viene desde dos mil trece

en dos mil siete se ratificó y se hizo un mandato por parte del parlamento vasco al gobierno vasco que no ha sido cumplido de todos modos señora artolazabal

y nos impide avanzar enormemente que es lo que está pasando aquí también si tuvieran o si están trabajando en un borrador estaría bien que los grupos parlamentarios aquí presentes lo supiéramos porque

de las diecisiete autonomías existentes trece ya tienen ley de juventud algunas desde el año dos mil dos hace dieciséis años sin embargo en euskadi seguimos esperándola cuáles no tenemos cantabria castilla la mancha extremadura y euskadi todas las demás ya tienen

cuya elaboración fue la primera recomendación de la ponencia realizada en dos mil trece

aquel mandato del que usted también hablaba aprobado en este parlamento en marzo de dos mil diecisiete y ante el inmovilismo de este gobierno nosotros nosotras insistimos es de vital importancia para el colectivo joven la elaboración de una ley vasca de juventud

por los derechos de todos los jóvenes y que tenga en cuenta las recomendaciones extraídas de la ponencia realizada durante estos últimos años porque el gobierno no debe hacer oídos sordos a los mandatos de la soberanía nacional que reside en este parlamento ni retrasarlos aún más de lo que ya está haciendo pónganse por favor manos a la obra con la ley vasca de la juventud que los representantes de la ciudadanía

estamos deseando hacerlo dejen de retrasarlo más y pónganse manos a la obra por favor eskerrik asko

es verdad señor bollain que somos de las pocas comunidades del estado que no tenemos una ley de juventud y eso se lo reconozco

también usted conoce que a la hora de definir y de pactar una ley en este

concitar ese apoyo ese consenso para que podamos sentirnos todos cómodos a la hora de aprobar una ley y en eso estamos y en eso ya venimos trabajando yo sí que les dije en la comisión cuando estuvimos hablando sobre otra serie de cuestiones relacionadas con la juventud

esta va a ser la tercera intentona señor bollain de poder sacar una ley de juventud vasca y espero que a la tercera vaya la vencida en la actualidad estamos finalizando eso borrador definitivo de lo que será la ley vasca de la juventud y esperemos que a lo largo del mes de febrero

el objetivo de esta legislatura con respecto al área de juventud es favorecer políticas activas que permitan la promoción y empoderen a la juventud hemos estado trabajando en el cuarto gazte plana que hemos presentado he solicitado comparecer en comisión para detallárselo pero la ley de juventud no va a ser la herramienta mágica

gracias señora presidenta buenos días a todos buenos días señora consejera en el último mes hemos asistido a varios

tres muertes ocasionados por menores de edad entre ellos el crimen de un matrimonio en el barrio bilbaíno

episodios que nos han conmocionado a todos a toda la sociedad vasca y además de la lógica alarma social hechos como estos ponen de manifiesto un evidente fracaso del sistema

sobre una cuestión que desde la fiscalía se viene advirtiendo desde hace tiempo desde la memoria anual correspondiente al año dos mil catorce se viene describiendo una cada vez mayor peligrosidad en los menores delincuentes y una ausencia total de valores en los mismos menores

menores de trece años de catorce años de dieciséis años menores que debieran de haber estado en el colegio

que la sociedad se pregunta por qué no estaban en el colegio por qué llevaban tanto tiempo desaparecidos de los centros de acogida y del colegio sin que nadie

la educación es un derecho reconocido a todos los niños y todas las niñas en al artículo veintisiete de la constitución

ante ese derecho y esta obligación qué hace su departamento cómo garantiza el ejercicio de ese derecho cómo controla la obligación

cómo comunica las ausencias de los centros escolares el pasado mes de octubre se firmaba un protocolo de actuación para ausencias no autorizadas en centros de menores un protocolo que fue firmado

y por las tres diputaciones pero departamentos como el suyo como educación no estaba señora consejera no cree que se debiera llevar más allá este protocolo y contemplar no solo las ausencias

llanos andrea egun on el derecho a la educación es uno de los derechos básicos de la persona reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente este derecho se hace efectivo por medio de la enseñanza obligatoria y se concreta en el deber de asistencia a clase

de derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma del país vasco deber que en el caso de los centros públicos

y en la resolución de la viceconsejera también de educación sobre la organización del curso en los institutos de educación secundaria azaldu ditudan ikasleen eskubideak eta betebeharrak

si lo que me viene hoy a decir a mí aquí y a toda la sociedad vasca es que se ha cumplido la ley y que se ha cumplido con lo que

lo que se establece en los protocolos lo que se establece en el decreto lo que yo le digo es que habrá que cambiar la ley y habrá que cambiar los protocolos y habrá que hacer algo más porque lo que está claro

derecho a la educación según las directrices según ese decreto que usted ha mencionado consiste no solo en formar en conocimientos

y en los casos en los que hemos hablado esto ha fallado estrepitosamente creemos que su departamento tiene mucho

mucho en este sentido el comportamiento de los menores en las aulas o las ausencias de los menores a las aulas debieran de ser la primera señal de alarma debieran de ser la primera señal que pusiese en alerta a las distintas instituciones implicadas

y tratarse las ausencias de los menores de manera distinta porque no es igual la ausencia de un menor que está en una familia estructura

estructurada como no es lo mismo la ausencia de un menor que está

y tampoco es entendible que el absentismo escolar tenga consecuencias para los padres y sin embargo parezca que no tenga consecuencias para la diputación foral ante los menores tutelados

que es necesario completarlos que es necesario una actuación suplementaria a la que se ha realizado no podemos quedarnos en que todo esto ha sido una fatalidad

ver qué podemos hacer para que situaciones como estas no vuelvan a suceder por el bien de los menores y por el bien de la sociedad eskerrik asko llanos andrea uriarte andrea

sí señora llanos como he dicho en mi primera intervención el servicio de inspección de educación realiza el seguimiento y el control de la asistencia

en primer lugar un control sobre los centros escolares los centros escolares deben informar antes del día cinco de cada mes del absentismo de sus alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los cinco y dieciséis años

halaber txostena bidali behar dio hezkuntza ikuskaritzari honako kasu hauetan en el momento en que se llega a un absentismo acumulado del cincuenta por ciento en cualquier curso de educación básica

trascurridos seis meses si el caso se ha detectado en cualquier otro curso de educación primaria

del veinte por ciento de absentismo es decir actuamos con un mayor control que lo recogido en el propio decreto de fiscalidad de menores del dos mil diecisiete que indica que con un absentismo que no supere el cincuenta por ciento durante más de seis meses no es suficiente para iniciar un procedimiento judicial adicionalmente la inspección de educación de cada territorio se coordina ininterrumpidamente con las respectivas fiscalías de menores el procedimiento establecido consensuado por las instituciones implicadas se sigue con todo el alumnado en el periodo de escolarización obligatoria con independencia de la naturaleza del sujeto que ejerce la tutela de la persona menor en relación al protocolo que ha citado el gobierno vasco firma desde el departamento de interior pero en nombre del todo el gobierno

por otro lado también de acuerdo con usted que vale son todas las medidas que

zigutela sin embargo los sindicatos y a pesar de que en diciembre algunos de ellos señalaron que las propuestas les parecía interesantes y que algo se había avanzado

y no un calendario cualquiera no anunciaron dieciocho días de huelga sumando

el objetivo de estas huelgas es el de presionar al departamento para que acepte sus exigencias sus reivindicaciones no lo digo yo no

quién sale perdiendo especialmente si finalmente se celebran esas huelgas

pierde el alumnado pierden las familias no pongo en cuestión que los sindicatos puedan convocar

la cuestión es dónde se pone el límite es justificable un día o dos de huelga quizá cuatro días de huelga y si se convoca una huelga indefinida hasta que finalice el curso habría que asumir que tienen derecho a ello sin analizar las consecuencias para miles y miles de estudiantes lo he repetido una y otra vez

y ese sitio se llama mesa de negociación tenemos que blindar a las escuelas de tanta presión que puedan desarrollar su actividad sin sufrir las consecuencias directas de unas reivindicaciones sindicales es necesario que todos actuemos con responsabilidad

y seguir trabajando por un acuerdo y si para ello es positivo que me desdiga mis palabras lo hago sin ningún problema señora ubera sin ningún problema

lo que me llama la atención es que usted en la justificación de la pregunta señala que en este momento es necesario promover iniciativas actuaciones y declaraciones que promuevan la colaboración y convocar dieciocho días de huelga es promover iniciativas y actuaciones que promuevan la colaboración

y más cuando sindicatos y departamento seguimos trabajando y acercando posturas sin ir más lejos esta semana hemos mantenido un total de tres reuniones con diferentes contenidos

no le hagamos sufrir con dieciocho días de huelga eskerrik asko uriarte andrea

comienzo confesándole que a veces resulta un poco extraño interpelarle o preguntarle porque

también le confieso que vamos a continuar insistiendo y perseverando a lo largo que queda de la legislatura porque la materia así lo requiere

al acuerdo de que las vicisitudes por las que atraviesa nuestro sistema educativa son francamente mejorables hay numerosos conflictos derivados de las relaciones o de la falta de relación e incapacidad de interlocución de su gobierno con los agentes educativos y además también

recientemente las alarmas en relación con las evaluaciones con los datos que resultan de las evaluaciones de nuestro sistema educativo y le digo esto porque el calendario legislativo que presentó su gobierno al comienza de la legislatura

tercer trimestre del año dos mil diecinueve la remisión a esta cámara de un proyecto de ley

por lo tanto señora consejera si su calendario legislativo dice literalmente que este proyecto de ley de educación va a ser necesario para seguir avanzando y profundizando en la calidad del sistema educativo vasco y que asimismo el objetivo es establecer una ley a través de esta ley

con los instrumentos necesarios para dar respuesta a sus necesidades de forma estable y duradera que comprenda elementos innovadores que reviertan en la mejora del sistema

etcétera cómo es posible que siendo tan importante su departamento y usted después de una legislatura y media

señor sémper a veces también usted me sorprende simplemente un detalle de su intervención inicial interlocución hay

hace falta la voluntad de las dos partes pero interlocución existe lehendakariak iragan irailaren hogeita batean politika orokorreko osoko bilkuran adierazi zuen moduan

eta hori ari gara esaten behin eta berriz en relación a la ley de educación que usted comenta también sabe que previo a la ley de educación también está recogido

alcanzar un acuerdo y en ello estamos trabajando eskerrik asko

señora consejera si usted fuera una recién llegada acabara de aterrizar en la consejería

todos podríamos entender que estamos trabajando en ello lo que sucede es que usted ya ha pasado una legislatura

esta legislatura ejerciendo la misma responsabilidad no nos puede aquí venir a decir que está en ello porque si hay un departamento importante en este gobierno muchos son importantes pero si hay uno que es estratégico porque afecta al presente y fundamentalmente al futuro de nuestra sociedad

y además cuando las amenazas que se ciernen sobre el propio sistema educativo que compartimos con usted que es un sistema educativo básicamente razonable y bueno si no se reforma si no introducimos las reformas para adaptarlos a una nueva realidad morirá de éxito

y hay que introducir reformas y nosotros lo que le hemos dicho en numerosas ocasiones en esta cámara es que puede contar con el apoyo del partido popular para introducir esas reformas y para materializarlas

bueno que no se lleva bien con los agentes educativos y que numerosas críticas se ciernen sobre su gestión

preséntenos un documento sobre lo que poder debatir si yo tengo la sensación de que estamos todos en esta cámara dispuestos a dejarnos pelos en la gatera para conseguir un nuevo sistema educativo a través de una nueva ley

con otras herramientas más modernas y mejores pero tiene usted que tomar la iniciativa porque usted lidera la política educativa en este país es que es usted la responsable y entonces claro resulta que según los datos del propio ivei mal en euskera mal en inglés

vamos a hacer algo ya señora consejera póngase las pilas que se le acaba el tiempo pero se le acaba el tiempo no porque no se lo demos nosotros que se acaba la legislatura y este proyecto de ley es fundamental

señor sémper usted sabe perfectamente cómo trabajamos en este país y que la base de todo es el acuerdo

una ley tan importante como es la de educación hace falta llegar a un acuerdo a un consenso entre todos los agentes políticos educativos y sociales

en este camino en el que estamos la pasada legislatura que usted dice claro no soy nueva

definimos con todos los agentes un modelo educativo que en estos momentos estamos implementando lo estamos implementando a través de un plan de mejora a través de los currículos que por cierto están recurridos

que en esta legislatura hemos iniciado un proceso que se ha presentado en esta cámara además de a los propios agentes se ha presentado en esta misma cámara de cómo estamos elaborando

porque no podemos traer una ley de educación simplemente pues porque se nos ha ocurrido elaborar un borrador no lo que queremos es una ley consensuada en la que todo el mundo esté a gusto y estamos trabajando en ese camino o sea no me venga a decir usted que no estamos haciendo nada otra cosa que usted no lo quiera reconocer otra cosa es que usted no quiera reconocer porque yo creo que

cuenta de todos y cada uno de los pasos que hemos ido dando elaboramos el modelo educativo lo trajimos a esta cámara los currículos fueron participados y se aprobaron dimos pasos para tener relación con los agentes educativos para empezar a buscar este acuerdo hemos traído a esta cámara qué proceso hemos puesto en marcha

sabe perfectamente que a esta cámara va a llegar una propuesta para llegar a un acuerdo y sabe perfectamente que está recogido

está usted dispuesto a trabajar por un acuerdo en educación

gracias señora presidenta buenos días consejeros bueno la verdad es que señor consejero

no es la primera vez que nos sorprende con declaraciones se acuerda aquello de los tulipanes que también fue ocasión de una pregunta en este pleno pero lo que ha motivado esta pregunta de esta parlamentaria

en las que comparó las colas existentes en una cafetería a la hora de comprar los juguetes en navidad o las colas que puedan haber en un partido de fútbol en un derby athletic alavés vamos a decir también alavés real o athletic real con las existentes

creo señor consejero que esas declaraciones fueron absolutamente inoportunas desafortunadas inapropiadas y además creo que usted coincidirá conmigo en que la asistencia a un partido de fútbol a una cafetería es un acto de ocio circunscribe en un acto de ocio por mera voluntad y acudir a un centro de salud a unas urgencias o a un por tener unos síntomas relacionados con la gripe

la comparación creo que hoy usted reconocerá en esta tribuna que no fue

y además es más porque en plena campaña de la gripe realizar estas declaraciones cuando

hay profesionales que están haciendo un especial esfuerzo para atender a todas las personas que acuden

sinceramente señor consejero nos parece un tanto frívolo y no nos parece que sea una cuestión con la que se puede frivolizar cuando a tenor de los datos que usted también se ha proporcionado a través de la red de vigilancia epidemiológica ha habido cuarenta y cuatro personas que han fallecido siete la última semana en relación a causas asociadas a la gripe cuando mil ciento setenta y tres pacientes han precisado hospitalización

consejero no espero de usted otra cosa que reconozca

adecuadas y que por lo tanto la comparación no vino a cuento para nada nada más muchas gracias

ha funcionado bien y esto es lo verdaderamente importante las declaraciones que usted ha citado es necesario contextualizarlas supongo que usted las habrá escuchado

y sabrá cómo se habló de los profesionales mezclar la mortalidad de la gripe con las declaraciones no tiene medio pase

coincidiendo con la epidemia gripal además de otras consideraciones expuse unos ejemplos más o menos afortunados probablemente desafortunados

en muchas ocasiones y en muchas actividades y que los centros sanitarios en periodo de mayor demanda las personas con procesos leves no lo olvide usted también deben esperar más fundamentalmente para que los profesionales

gracias señora presidenta bueno yo he querido entender de alguna forma sus disculpas señor consejero y el reconocimiento de que sus declaraciones

muy afortunadas ha dicho más o menos desafortunadas yo recalcaría absolutamente desafortunadas pero yo creo que bueno

una rectificación que yo creo que es adecuada porque sus declaraciones no estuvieron bien y sobre todo además tuvieron un eco no solo en los medios locales y regionales sino en otros medios

nacional yo para nada he cuestionado los dispositivos en relación a la gripe es más he resaltado y alabado la labor de los profesionales que todos sabemos que además en la campaña

que también hay profesionales que están de vacaciones y que el cupo de pacientes y la asistencia de pacientes

señor consejero me alegro de sus disculpas y esperemos que cuando vuelva haber otros episodios de gripe

sobre todo garantizando la calidad del servicio besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

celebro su preocupación por la gripe y por el dispositivo establecido que es lo verdaderamente relevante este año hemos registrado un pico máximo de cuatrocientos dieciocho

con mayor número de personas afectadas en atención primaria

como de los puntos de atención continuada en los hospitales se han reforzado las urgencias

se ha habilitado una dotación extraordinaria de quinientos veintinueve camas además de que este año por primera vez

la epidemia con las urgencias y las camas del nuevo hospital alfredo espinosa abiertas también hemos concertado camas en centros sanitarios de los tres territorios

el transporte sanitario a día de hoy aunque la epidemia según los últimos datos empieza a descender mantenemos el plan de contingencia activo ya que todavía

me gustaría resaltar especialmente el trabajo de la comisión de seguimiento del plan que desde el inicio de la epidemia todos los días ha compartido la situación de cada centro

altas camas disponibles incidencias etcétera para intentar garantizar una respuesta adecuada quiero también agradecer la labor y profesionalidad del personal sanitario tanto los centros sanitarios privados

de atención primaria y también de las farmacias y de la red de transporte sanitario que desde sus diferentes ámbitos han trabajado y continúan trabajando para combatir la gripe gripearen kontingentzia planak

popular sobre el futuro de ikusmer el observatorio de la distribución comercial de euskadi tal como dice el decreto de creación siendo el año dos mil seis y dentro del plan de competitividad empresarial e innovación

donde el gobierno de aquel momento se compromete a orientar sus políticas en la mejora de la competitividad del tejido empresarial mejora de la eficacia de las políticas institucionales

dado que el comportamiento de los precios en aquel momento estaba generando una creciente inquietud tanto por su impacto en la inflación general como en la competitividad de la economía en esta cámara en el año dos mil seis

a crear un organismo capaz de proporcionar de forma ágil información actualizada sobre la evolución del sector comercial vasco

como para el propio sector a la hora de realizar su planificación estratégica es para esto por lo que mediante el decreto cincuenta y seis barra dos mil siete de veintisiete de marzo

modificado posteriormente en dos mil doce para hacerlo más ágil hasta este momento hasta el dos mil siete la información en este asunto la aportaba eustat

de manera que el procesamiento de los datos y resultados se presentaba con dos años de desfase con lo que los resultados que se presentaban antigua de la situación del comercio y no la del momento

hecho que se sigue produciendo en eustat en la planificación que realiza por ejemplo en las publicaciones que realiza

facilita la situación del comercio en el año dos mil quince casi dos años de diferencia entre la situación que presenta y el momento de publicarlo

desde que se empieza el trabajo hasta que se publica ikusmer se crea para solucionar esta problemática principalmente como una herramienta específica que analiza

de la evolución del sector tanto al gobierno como al comercio vasco detecta tendencias del sector informa sobre innovaciones calcula los indicadores que comprueban sí los planes directores de comercio están desarrollándose de forma positiva para el sector asesora e imparte ponencias tanto al sector como a los técnicos de la dirección de comercio elabora el barómetro de comercio y el barómetro de demanda y todos aquellos

que surgen por la coyuntura del momento además de elaborar semestralmente el informe del comercio vasco

están los grupos de trabajo que periódicamente se reúnen con el objeto de propiciar debates con expertos provenientes de distintos campos de la empresa de la universidad de la administración pública

debates sobre aspectos que afectan al sector de la distribución comercial y poder extraer una fotografía de la realidad del sector y plasmarlo en los informes que sean útiles

planes estratégicos de las empresas del sector en la página web del observatorio se ha podido ver ikusmer están colgados

de gran interés además su página ofrece un amplio

importante donde se difunden contenidos de actualidad

tendencias que ayudan al crecimiento del sector el decreto de creación el que he citado cincuenta y seis barra dos mil siete fija el funcionamiento del observatorio actuará dice mediante el pleno con treinta vocales la modificación de dos mil doce los deja en veinticuatro la comisión ejecutiva con siete miembros que el decreto del dos mil doce en el gobierno del señor lópez lo y deja la secretaría técnica inicialmente tres trabajadores luego pasa a dos entre dos mil siete y

que mediante un proceso de selección contratan tres personas para desarrollar las labores asignadas a la secretaría técnica de ikusmer y cuya

de la cámara de comercio de bilbao los tres trabajadores una administrativa un técnico y una directora diseñaron y pusieron en marcha el observatorio del comercio y presentaron un plan de actuación

aprobó en ese periodo dos mil siete dos mil nueve el pleno del observatorio se reunió dos veces

mostró el altísimo grado de satisfacción tanto en el sector como el trabajo desarrollado en aquellos dos años de inicio en el año dos mil diez en el gobierno del señor lópez

se decide renunciar al convenio con las cámaras vascas y dice que probablemente

en esta situación de impás se decide sacar a concurso público el servicio de la secretaría técnica para que sea desarrollado por una consultora

se había anunciado en un momento y se ha mantenido el concurso bianual hasta el dos mil diecisiete que ha sido para un solo

año se viene atendiendo los trabajos de la secretaría técnica

de que los concursos han sido ganados por diferentes consultoras todas han contratado a las dos personas que componen la secretaría técnica eso que el concurso no exigía la subrogación

y la señora muela han convocado el pleno del observatorio es presidenta del pleno la viceconsejería y por tanto a quien corresponde convocar

y coordinando sus trabajos a través de reuniones mensuales de seguimiento con el director o directora de comercio del momento

adscrito al concurso del observatorio y el personal del observatorio

no ha sido un problema para el desarrollo del trabajo de ikusmer convocatoria que como le digo corresponde a la viceconsejería no a la secretaría técnica es el año dos mil diecisiete el que ha sido más complejo extraño y raro en este observatorio un año complicado porque ikusmer primero se empieza

primero se pierde tiempo con el concurso adjudicando el trabajo a una empresa que no acreditó la experiencia exigida

que recurrió esto supone un parón de los trabajos reincorporándose los trabajadores de la secretaría técnica a finales de julio de dos mil diecisiete

con la adjudicación mediante concurso como se venía haciendo dado que el proyecto requiere estabilidad y apuestan por la vuelta a la contratación a través de las cámaras de comercio más tarde se les dice que ikusmer desaparece para que a reglón seguido

es el veintiocho de diciembre cuando se les asegura que en una semana se incorporarán al servicio y después qué ha llegado la no respuesta la no contestación la no atención eso es lo que se ha producido los trabajadores de la secretaría técnica

los trabajos que ha realizado este observatorio porque hay que decir que ha sido un observatorio modélico que fuimos pioneros porque hubo momentos que este gobierno era pionero efectivamente

elegidos para las investigaciones de universidades de todo el mundo sus trabajos son magníficamente valorados por el sector del comercio su página web tiene

al mes atienden consultas de ayuntamientos como decía antes técnicos de comercio alimentan la web

un repositorio de información con más de cuatrocientos estudios y veintisiete mil noticias atienden y colaboran con todos los agentes del sector

plan director de comercio no se les incluye alguien dio la orden de que no se les incluya

su trabajo en estos diez años no tiene ningún valor para

una herramienta referente para el sector del comercio una herramienta económica muy económica probablemente la herramienta más económica de toda la administración vasca

al año díganme una publicidad que ha hecho el gobierno el departamento de comercio para

un bono de navidad tarde y mal señorías señor consejero
cuál es el futuro de ikusmer eskerrik asko lópez de ocariz andrea retortillo jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta señorías señora lópez de ocariz hace usted la pregunta

en treinta segundos se responde bien ha ido usted haciendo un recorrido por ikusmer un poco a saltos así que trataré

de exponer mi posición al respecto contando efectivamente cuál ha sido

desde el momento de su creación cuál ha sido el régimen de funcionamiento de ikusmer cuál ha sido el régimen de funcionamiento en términos de producción de información en tanto que observatorio de la distribución comercial de euskadi

o los recursos de información estadística de que

o trata de disponer efectivamente ikusmer se creó en dos mil siete mediante un decreto un decreto que fue modificado

dos mil doce pero una reflexión de modificación que provenía de finales

que respecto de un enfoque que había sido el de la mirada al pasado

al análisis de tendencias que al análisis de resultados en cualquier caso aquel primer decreto

nos dice algo sobre cuál era el objetivo o la intención a la hora de crear este observatorio esta disposición final primera señalaba

de la distribución comercial de euskadi será atendido con los medios materiales y los recursos humanos del departamento en realidad la primera opción en relación a la creación de este órgano de información estadística

era la creación de una unidad dentro del departamento que suministrara información estadística al departamento y al sector en relación a sus políticas de comercio esta opción fue desechada

fundamentalmente por disponibilidad presupuestaria o porque cambió el enfoque

nuevo se buscaron otras fórmulas y efectivamente la primera fórmula a la que se acudió

este servicio que había sido aprobado mediante decreto de gobierno a pesar decía de la disposición

decreto después se abandonó lo que usted no ha contado es que la oficina de control económico al año siguiente desaconsejó

un convenio con cámaras de comercio desaconsejó o informó negativamente el recurso a un convenio con cámaras de comercio para mantener este servicio

a partir de ese momento a partir del año siguiente se recurre al régimen de concurso público para la secretaría técnica del observatorio respecto a esto también tengo que hacer una precisión pero

de manera que a partir del año dos mil diez se

esta secretaría técnica del observatorio que le diré que en aquel primer año supuso

euros ese concurso se repitió al año siguiente en el dos mil once se prorrogó en dos mil doce

se volvió a hacer en dos mil quince se prorrogó en dos mil dieciséis y se volvió a sacar en concurso para el ejercicio del año dos mil diecisiete pero con una variación a las cantidades si habíamos empezado con doscientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta euros para el año dos mil quince el concurso salía con un importe

del importe a esa secretaría técnica era de ciento setenta y uno mil doscientos quince euros rebajado sensiblemente aunque no habían cambiado supuestamente las funciones de esta secretaría técnica

estaba convocado desde septiembre del año dos mil dieciséis y se adjudica en el momento justo en el momento previo

del nuevo departamento entonces de turismo comercio

y me encuentro con que esa adjudicación que se realiza a finales de noviembre se recurre en enero y el procedimiento primero por el órgano administrativo de recursos contractuales

que se habían presentado nos lleva a que no existe secretaría técnica de este observatorio hasta

no contamos con este observatorio por una

en función del régimen que se sigue de concursos públicos por cierto no consta pregunta al respecto en relación a esa paralización de este servicio tan importante

como sabe además en ese momento en la creación del nuevo departamento este departamento en tanto que tiene operaciones estadísticas tiene la operación estadística de de frontur y de familitur

obligatorio la creación es un nuevo departamento pero que tiene operaciones estadísticas la creación de un órgano estadístico algo que a partir de la aprobación del decreto de estructuras que se aprueba como sabe también por una cuestión de plazos y de entradas

algo que comenzamos a realizar a partir del mes de junio es decir un órgano estadístico propio del departamento para la creación de estadísticas que se justifica en la existencia de operaciones estadísticas es verdad que las tres vinculadas al ámbito de turismo pero

tener una visión también por una cuestión que usted ha mencionado del ahorro de recursos al conjunto de los sectores una cuestión más

con la secretaria técnica el mismo decreto al que usted hace referencia establece

uno es el foro consultivo el pleno del observatorio otro es el comité ejecutivo que efectivamente decae en la modificación del decreto de dos mil doce

la secretaría técnica las funciones que usted adjudica en su interpelación al observatorio son funciones que el decreto original y después se mantiene

sino al foro al foro consultivo este foro consultivo que es el que establece una función de dirección de los contenidos del observatorio no la secretaría técnica la secretaría técnica asiste al foro

de las funciones que tiene encomendadas el observatorio qué situación es con la que me encuentro con la paralización

de ikusmer por lo tanto considerando el conjunto de situaciones primero una situación de concurso público que había demostrado

que no era oportuna en tanto que podía paralizar el servicio durante la mitad del año sin que insisto constara pregunta ni interpelación al respecto segunda el órgano de dirección

muchísimo tiempo y no establece cuáles son los contenidos es más usted ha hablado de grupos de trabajo los grupos de trabajo son del pleno no son de la secretaría técnica por lo tanto me encuentro con una situación en la que la secretaría técnica

el no funcionamiento según el propio decreto del conjunto del observatorio vasco de la distribución comercial es en ese punto y además ante la creación de un órgano estadístico propio desde mi punto de vista en lugar de seguir la inercia y haber vuelto a reconvocar un concurso y haber seguido exactamente con la misma inercia que probablemente hubiera evitado su interpelación del nueve de enero en esa situación desde mi punto de vista y además frente a las propias reacciones que recibo del sector

de comercio cuando lo que abrimos es una reflexión sobre el órgano estadístico de creación de información las funciones siguen en vigor no hemos decidido digamos eliminar ikusmer pero desde luego creo

plazo de tiempo posible una reflexión en profundidad sobre
las necesidades y sobre la utilidad de este órgano eskerrik asko retortillo jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

pregúnteles lo que ha hecho la secretaría técnica con los directores de comercio y alguna directora de comercio anterior tiene ahora en su gabinete que le podrá explicar perfectamente

con los técnicos adjuntos del departamento para el observatorio por lo tanto premio para la secretaría premio para la secretaría vale pero usted como dice se ha encontrado un problema pero qué ha hecho usted desde junio

al día de hoy qué ha hecho su departamento primero necesitamos estabilidad en el observatorio por lo tanto vamos a volver a contratar a través de las cámaras de comercio

eso lo tengo luego se desdice que ikusmer va a desaparecer

pedirles un plan de actuación ikusmer para dos mil dieciocho

ven cómo el plan director de comercio no incluye ikusmer luego el veintiocho de diciembre

se reanudaba el trabajo de la secretaría oiga bandazos y criterio no tomado no señor consejero lo que ha demostrado su departamento en el área de comercio ha sido una desorientación y por qué porque no ha estado comercio en su agenda comercio este año no ha estado en su agenda ha tenido otro trabajo yo no digo que no haya trabajado pero comercio no ha estado porque mire hoy vamos a la página de ikusmer y vemos información de dos mil diecisiete

próximos eventos no hay eventos próximamente disculpen las molestias oiga pero qué estamos

no hay una manera de resolver esto de otra manera no dando esta imagen

qué ha pasado aquí qué tenemos quién está detrás de esto administración está llevando esto hombre yo creo que las cosas que necesitarán reflexión pero antes de destruir lo que tenemos habrá que tener una alternativa

pero eso se contrapone lo que tengo lo cambio por lo que he elegido y no pierdo no me dice usted que los plazos que se han perdido sí sí pues ahora en ese periodo de reflexión ya veremos a ver va a tener su idea claro que tiene su idea sé perfectamente cuál es su idea

sé perfectamente lo que va a hacer ahí claro que sé sé muy bien pero oiga para eso

y la actuación que está teniendo conforme o respecto a esta herramienta creo que no es la adecuada creo que ikusmer las personas que han dedicado tanto tiempo a esto

un capital humano importantísimo con un conocimiento importante habrá gente con más conocimiento no tengo ninguna duda

mire el sector del comercio y el último dafo que está colgado en el dos mil diecisiete

nos habla de cómo tenemos la realidad del comercio de la necesidad que tenemos de herramientas de red y apoyo porque a todos nos gustaría tener un comercio

pero es que los datos y el dafo nos dicen pues que es que tenemos las herramientas muy básicas antiguas

tecnológicamente muy atrás y el desfase se nos está haciendo por lo tanto

no lo puedo entender y señor consejero creo que

claro que sí pero no dejemos tirado esto hemos

la página la herramienta la hemos desbaratado y ya traeré otra cosa nueva

me sorprende este proceder entienda que me sorprende como le decía creo que tenemos que poner el comercio en la agenda del departamento en la agenda pero como algo muy importante usted sabe que el comercio junto con la hostelería son los ejes que vertebran los cascos urbanos de nuestras ciudades y nuestros pueblos no es cualquier cosa el comercio el turismo es muy importante

hacen una función social muy importante aparte de la actividad económica

si vamos a hablar del trabajo de la secretaría técnica o incluso de los trabajadores podemos estar de acuerdo de hecho en buena parte han suplido

ineficiencia en el funcionamiento sobre todo en los últimos tiempos del observatorio de distribución

la necesidad de una reflexión al respecto una necesidad que no viene solamente por las ineficiencias provocadas por ejemplo por el régimen de concurso

los tiempos cambian que es una barbaridad y también en esto también en la información estadística

también a la recopilación de datos sobre el comercio efectivamente el comercio es muy importante por eso le he dicho antes

era dejarme llevar por la inercia porque la inercia fácil era repetir el proceso del año pasado

porque esto que me habla usted del parón hoy estamos a dos de febrero

presentando esa interpelación pero es que la tiene registrada el nueve de enero señora lópez de ocariz el nueve de enero gran parón y qué pasó el año pasado que hasta junio no hay observatorio y no hay pregunta ni interpelación ni nada que se asome

el nueve de enero usted me plantea una pregunta sobre la continuidad o no del observatorio cómo sabía usted que no podía haber habido una convocatoria el día doce pues eso pues eso

y es tan importante contar con una buena información porque efectivamente está en un contexto de riesgo de múltiples riesgos que amenazan

de un sector que es vital no solamente en términos de actividad económica sino sobre todo en creación de cohesión social y

de vida de barrio de vida de nuestros pueblos de nuestras ciudades de nuestras calles es tan importante que precisamente por eso no me he dejado llevar por la inercia y además le digo que eso se lo ha saltado además le digo que el departamento en tanto que el departamento de nueva creación y departamento

esperando el informe de la oficina vasca de estadística

en la elaboración de ese órgano estadístico con el que no contaba comercio con el que no contaba turismo porque no tenía ese estatus departamental anteriormente y ahora lo va a tener creo que eso es

independientemente de que si quiere desde aquí lo digo la labor de la secretaría técnica en buena parte ha suplido otras ineficiencias

pero no podemos contentarnos con eso era necesario es necesaria esa reflexión y precisamente porque estoy preocupado por las necesidades del comercio es por lo que

lo he hecho he decidido parar reflexionar y a partir de ahí establecer

de información estadística para el sector del comercio en el departamento por ejemplo usted sabe perfectamente que el estadístico del departamento

saca información la información que suministra el propio eustat sobre las encuestas de turismo

sobre comercio pero por alguna extraña razón quedó subcontratado quedó fuera de las obligaciones estadísticas del propio departamento bien

en la nueva creación de este órgano estadístico propio del departamento y obligatoriamente eso me lleva a reconsiderar

cuál va a ser la estrategia de producción de información también externa por parte del departamento para el sector de comercio nada más muchas gracias

eguerdi on beltrán de heredia andrea emakunde ha presentado el estudio experiencia de la detención policial en las mujeres de la comunidad autónoma del país vasco junto con sus autoras lohizune

que se evidencian diferencias de género en cómo la policía identifica y resuelve

sean diferentes en función de si la persona detenida es hombre o mujer eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu anderea señora arana con relación al

que está dirigido a analizar los procedimientos relacionados con la detención de mujeres efectivamente la aportación

estudio de hecho se centra principalmente en entrevistas personales semiestructuradas a nueve

a once profesionales de la abogacía y a diez entidades y asociaciones civiles incluso desde el punto de vista de los objetivos del estudio es una investigación

las autoras del documento marcan una serie de objetivos cuatro en concreto

de las personas y concretamente de las mujeres que son detenidas para saber cuál

por otra parte conocer las circunstancias de la detención para saber qué tipo

antes de pasar a disposición judicial con el fin de ver si en ese trato policial pudieran darse sesgos de género de clase social de procedencia geográfica o de grupo étnico y finalmente

así pues las propias autoras del estudio subrayan que además de las condiciones de género las mujeres pueden verse afectadas por otras cuestiones de desigualdad y exclusión cuando usted ha querido poner el foco en los estereotipos de género

a pesar de ello es evidente que el estudio abarca cuestiones mucho más amplias y cuestiones que afectan

considero que este estudio recoge y recoge bien también los aspectos positivos que ya se aplican en estos

que vamos a analizar para su posible implementación

en implementar la perspectiva de género en las políticas y actuaciones policiales eskerrik asko eskerrik asko

leído está ampliamente consensuado que es imprescindible incorporar perspectiva de género a las políticas de seguridad sin embargo tenemos unas políticas de seguridad que la actualidad dedican un porcentaje no adecuado de sus esfuerzos y recursos para

la justicia social la igualdad o la sostenibilidad como pueden ser la corrupción delitos fiscales contra los derechos laborales violencias machistas delitos por odio por motivos de raza

medioambientales los principales organismos internacionales han expresado la necesidad de estudiar y analizar las políticas de seguridad y la situación penal de las personas desde una perspectiva de género este informe que hoy nos ocupa de alguna manera llena un vacío que el departamento de seguridad no está cubriendo

recomendaciones de políticas públicas orientadas a la acción y basadas en las necesidades especiales de las mujeres en su calidad de reclusa o delincuente una década más tarde se acordaron las reglas de van gogh que imagino usted conocerá

porque en el proceso de presupuestos ya nos quedó claro que las políticas de igualdad y erradicación de las violencias machistas no están entre las prioridades de su departamento para empezar

en el punto seguridad y prevención civil no hay ni una sola mención ni una sola a políticas de igualdad ni violencias machistas y como todas sabemos lo que no se nombra no existe

y economía que acompaña al proyecto de presupuestos el departamento de seguridad no cumplimento los formularios para analizar la perspectiva de género en los programas presupuestarios

el impacto de género y si hablamos de la academia vasca de policía y emergencias más de lo mismo no aportó ni pertinencia ni relevancia ni entregó el mencionado formulario supongo que conocerá el decreto del gobierno vasco aprobado en dos mil diecisiete que regula el impulso y coordinación de las políticas de igualdad en los departamentos del gobierno vasco

arkaute no ha realizado los trámites necesarios no ha reservado presupuesto para la creación de la unidad administrativa para la igualdad señora

diez años de incumplimiento del decreto diez años le parece que esto es tener una perspectiva de género en su departamento pero esto no es todo si nos ponemos a analizar las políticas internas del departamento queda claro que es un departamento altamente masculinizado

y lo mejor de todo el cien por ciento de las excedencias para el cuidado de hijos e hijas en su departamento el cien por ciento han sido solicitadas por mujeres

más o menos de lo mismo no cree usted que se necesita revisar y rediseñar las políticas de recursos humanos y cultura organizacional no cree usted que hay que hacer perspectiva de género en su departamento tenemos un modelo que hasta ahora ha sido excluyente para las mujeres de la institución los datos son indiscutibles y un modelo que también compromete la calidad de las actuaciones de la ertzaina con la ciudadanía como han quedado en evidencia en este informe me podrá decir que la masculinización

policiales mal de muchos consuelo de tontos nosotras le décimos que este gobierno tiene recursos para

señora arana algunas de las consideraciones de este estudio que también ustedes han leído forman parte como también conocerá usted espero que conozca de los compromisos se reflejan en el plan de igualdad del departamento y en el propio plan de igualdad de la academia por ejemplo la modificación de la ley de policía vasca para establecer elevar el porcentaje de mujeres

un tema en el que también como creo que usted ya conoce

reiterativa en las últimas convocatorias de las nuevas promociones

hoy hay que corregirlo a futuro las últimas promociones ya marcan esa tendencia y hemos alcanzado un veinticinco por ciento de la incorporación

de relación interna como en el ámbito de la relación externa y la perspectiva de género además de otras materias relacionadas con la igualdad con la no discriminación con la interculturalidad

en los cursos de acceso a la policía vasca como en los de ascenso y especialización que se imparten en la academia vasca de

en cualquier caso al hilo de la problemática que plantea el estudio sobre el colectivo de mujeres que son objeto de detención le aseguro que analizaremos todas y cada una de esas cuestiones para incidir en la mejora de la atención y en la mejora de los procedimientos de detención más aún al tratarse de como usted también conoce del planteamiento del programa de detención que está sujeto a estándares

enviando mis más sinceras condolencias y las del resto del gobierno vasco

de los trabajadores fallecidos ayer mismo y decir que por nuestra parte tanto osalan como la inspección de trabajo van a actuar como actúan en estos casos

grave muy grave o mortal que es llegando hasta las últimas causas de estos accidentes para evitar que se vuelvan a producir

desde el día en que asumí la máxima responsabilidad al frente del departamento de trabajo y justicia que es que toda persona trabajadora

laboral en las mismas condiciones de salud con las que partió el accidente laboral cualquiera que sea su gravedad es un fracaso colectivo que implica de diferentes maneras a toda la sociedad vasca en primer lugar denotará

hay fallos en lo que al desarrollo de la cultura preventiva se refiere es en este aspecto donde osalan juega un papel decisivo la formación de los delegados y delegados de prevención y la difusión

es una función que desempeña con total responsabilidad a partir de ahí las competencias están bien establecidas y recogidas en la ley de prevención de riesgos laborales del año mil novecientos noventa y cinco que deja claramente establecido que es el empresario

de la formación e información en lo que a seguridad se refiere por lo tanto son los empresarios quienes tienen que incorporar el valor de la prevención de riesgos

perfectamente asumidos como son la rentabilidad la competitividad o la innovación pero dicho esto

y en primer lugar a las instituciones como he dicho osalan e inspección de trabajo por ello desde el departamento ejercemos además de la labor inspectora obligando a corregir y si es preciso sancionar

por otra parte se investigan todos los accidentes como he dicho graves muy graves y mortales que se producen en euskadi para después analizar y sacar las conclusiones oportunas y poder diseñar nuevas propuestas de prevención que pueden aplicarse en un futuro estas son las medidas que ponemos en marcha tratando de mejorar constantemente y realizando una espiral difusión inspección investigación y nuevas medidas que siempre incorpora mejoras por último como representantes de la sociedad implicada con la reducción de los accidentes laborales tenemos que contar con los sindicatos y especialmente con lo delegados y delegadas de prevención

de la difusión de la cultura preventiva y de la adopción de medidas de seguridad en cuanto al aspecto cuantitativo que por supuesto nos ocupa y preocupa voy a señalarle que en un asunto como este

ya que la memoria de osalan está a punto de concluirse el índice de incidencia que es el número de accidentes laborales por cada mil personas empleadas ha bajado

por lo que sin afán de ser triunfalista creo que muestra una evolución positiva indudable eskerrik asko

y cuando se habla de precariedad yo tengo que hablar de negociación colectiva y tengo que hablar de calidad en el empleo y que desde luego esa negociación colectiva se tiene que dar con respecto al número de inspectores sí que decirle que dentro de la comunidad autónoma hay cincuenta inspectores y subinspectores más cincuenta y dos que pertenecen

al resto del estado eskerrik asko san josé anderea

en el pliego para la adjudicación del servicio de justicia restaurativa no se ha recogido la obligatoriedad para la nueva empresa adjudicataria

los derechos de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores que vienen desarrollando el trabajo de mediación intrajudicial hasta ahora nosotros pensamos por eso nos gustaría saber por qué no lo han hecho pensamos que tomando esta decisión que

por otro tipo de posición están dejando en la estacada a unas trabajadoras y trabajadores que usted mismo ha señalado que vienen realizando una labor excelente en los últimos años por eso queríamos conocer esta cuestión

hernández en el departamento de trabajo y justicia gestionamos a parte de este servicio otros dos servicios de cooperación con la justicia que son el servicio de atención a la víctima y el servicio de gestión de penas en el caso de los dos últimos mediante contratos surgidos de los correspondientes

el servicio de justicia restaurativa intrajudicial es un nuevo servicio que tiene su antecedente más inmediato en el servicio de mediación intrajudicial

en todos los juzgados de la comunidad autónoma vasca y mediante convenio entre la administración y la empresa adosten el gobierno vasco apuesta por los sistemas alternativos a la justicia formal penal desde el año dos mil siete cuando se comienza a ofrecer la mediación intrajudicial

en el estado en este tipo de servicios y que el reconocimiento internacional es notorio y voy a detenerme un momento en lo que es la mediación la mediación es una parte o una técnica de la justicia restaurativa pero no puede asimilarse mediación o justicia restaurativa

es una medida complementaria y esta incardinada en un proceso judicial buscando una solución mediada al conflicto judicializado

para la adjudicación por contrato del servicio de justicia restaurativa intrajudicial que no va a desempeñar las mismas funciones desempeñando el actual servicio de mediación intrajudicial con ánimo de mejorar el servicio y continuar en la línea con los países más avanzados en europa cuando se ofrezca este nuevo servicio algunas regiones de noruega y la comunidad autónoma vasca serán las únicas que tengan

en el que además de la técnica de mediación se utilizaran otras técnicas como los círculos y conferencias que van a portar a la inclusión en el proceso de afectados en la sociedad por un delito o conflicto

en conclusión señor hernández hablamos de un nuevo servicio y esta es una razón para no incluir en las bases la cláusula a la que usted se refiere

sí gracias señora consejera en nuestra opinión creemos que ustedes se están escudando en un cambio de nombre

para evitar entre otras cosas o para conseguir que la nueva empresa adjudicataria entre como se suele decir con las manos libres respecto a obligaciones con trabajadores y trabajadoras que ya venían haciendo ese trabajo nosotros pensamos

que el elemento troncal de la justicia restaurativa es la mediación y en el pliego de concurso se habla

a lo que se refiere es mediación y efectivamente se añaden un par de objetivos más que usted ha mencionado los círculos y conferencias por lo tanto estamos hablando de un mismo servicio ampliado que se venía realizando por trabajadores y trabajadoras en esta comunidad autónoma de manera

usted misma ha dicho en más de una ocasión por eso no entendemos que su departamento pudiendo haberlo hecho

la obligatoriedad de subrogación de las condiciones de trabajo de estas trabajadoras

nosotros estamos convencidos de que es el mismo servicio usted misma ha dicho también

que antes tenía otro nombre mediación penal que después se llamó mediación intrajudicial es decir ya ha tenido dos nombres pero es el mismo servicio y ahora

nos parece bien que se le cambie el nombre pero sigue siendo el mismo servicio y por lo tanto no hay razón para dejar en la estacada a quienes venían realizando esta labor

mediante convenios ni mediante adjudicaciones pero ustedes han decidido adjudicar un servicio nos parece bien lo que no nos parece bien es que pudiendo optar

la obligación de subrogación de estos derecho no lo hayan hecho y es lo que queremos nosotros saber

no es razón suficiente si como usted defiende es un nuevo servicio quizá usted pueda tener razón aunque no lo compartimos en que no tengan obligación de recogerlo

podían recoger perfectamente el derecho de subrogación de las condiciones de trabajo de estas trabajadoras y trabajadores que se van a quedar seguramente en la calle

aquí fuera se hayan concentrado cinco sindicatos no uno ni dos cinco sindicatos de diferentes colores en contra de una decisión de un departamento dirigido por una consejera socialista y nosotros pensamos que ustedes podían haber optado por una cuestión diferente y que se han colocado en el lugar equivocado muchas gracias

señor hernández en mi primera intervención le he explicado una de las razones la fundamental para mí pero no la única de para no haber incluido la cláusula de subrogación en las bases del concurso pero voy a explicarle otras

correspondiente pretendemos que haya más transparencia en la adjudicación que se establezcan claramente las condiciones de los trabajadores

a qué convenio van acogerse si resultan prestatarios del servicio algo que no se exigía en el convenio de prestación

han estado acogidas a más de un convenio colectivo no obstante tengo que decirle que según el texto

al margen de lo expresado en los pliegos del concurso considero señoría un éxito que se hayan presentado al concurso cuatro empresas

pues no había en nuestra comunidad experiencia en la materia no le quepa la menor duda de que nuestro objetivo es ofrecer a la ciudadanía

y que cuenten con unas condiciones dignas de trabajo eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut

en el marco de las conversaciones de ginebra sobre siria involucrando a todas las partes incluidas los kurdos